horiei zuzendu diegu plana decía por tanto que el plan de internacionalización es uno de los elementos clave

hay que planificar muy bien en qué estadio en qué lugares acompañado de quién y en qué momento se debe realizar por tanto a nuestras pequeñas y medianas empresas va encaminado este plan y lo que estamos observando es que a lo largo de los años nuestras exportaciones ya son el treinta por ciento

economía vasca que las exportaciones en euskadi este año datos también cerrados de dos mil diecisiete

nuestra aportación bastante más baja que han crecido más de un diez por ciento por tanto es un camino que se ha emprendido con éxito pero tenemos que analizar muy bien en qué mercados queremos estar presente

el área más cercana geográficamente y el área más lejana en lo que hace referencia al mercado cercano europa sigue siendo uno de los ámbitos estratégicos donde más exportaciones donde más internacionalización se está dando alemania francia

no tenemos que olvidar que tenemos que competir con empresas muy similares a las nuestras y que tenemos que hacerlo muy bien sin olvidar que desde luego hay otros mercados

por lo tanto estamos presentes en más de setenta países con oficina propia o a través de personas que trabajan para nosotros

a tener lugar en milán estamos trabajando muy seriamente para que sea en junio y se ha demostrado que las oficinas abiertas en alemania y en londres en la pasada legislatura en londres recientemente un fruto muy importante alemania ha pasado a ser el primer mercado de exportaciones en europa hemos tenido que ampliar la oficina por tanto creemos que italia siendo un mercado que económicamente es muy similar al nuestro en cuanto a estrategia en cuanto a áreas de actividad sin olvidarnos de todo nuestro
ris tres creemos que es un ámbito en el que tenemos grandes oportunidades y que tenemos que trabajar a partir de ahora eskerrik asko eskerrik asko tapia

onartzeko moduko irtenbide justu bat bilatzera behartzen baitu expreso por lo tanto mi respaldo a esta propuesta integral y al inicio de esta nueva etapa que permita

opciones basadas en el respeto de la dignidad inalienable de las personas y los pueblos que sean defendidas de forma pacífica y democrática eskerrik asko

hice y haré todo lo posible para evitarla esta aplicación responde a una excepcionalidad que conduce a una situación anómala desde el punto de vista democrático

supone romper el contrato social entre las personas electoras y las electas

supone prolongar un escenario excepcional opuesto a la normalidad democrática de hecho su desactivación será el indicador más firme de recuperación en una senda de normalidad democrática cataluña necesita un nuevo gobierno de la generalitat y sólido que recupere las instituciones de su autogobierno que abra un nuevo tiempo de diálogo y que contribuya a superar el actual bloqueo espero que ahora

el dieciocho de enero el gobierno vasco diputaciones y eudel firmaron un pacto por la infancia y la familia con la presencia de los diputados el presidente de eudel y usted mismo señor urkullu cinco

protagonistas absolutos y una sola mujer en la esquinita de la foto

de su gobierno con las políticas de igualdad con esta foto y algunas otras otro día hablamos de la foto del concierto económico en el arriaga

podría explicarlos cuáles fueron los motivos que le llevaron a organizar un acto de estas características

dejando a la única mujer presente arrinconada en una esquina de la foto eskerrik asko arana

a todas las instituciones vascas y junto a quienes firmamos el pacto participaron en el acto la consejera

las tres diputadas forales y la directora de eudel junto a las personas representantes de las asociaciones y entidades sociales que forman parte del consejo vasco de familia

todas y todos estamos comprometidos con la igualdad y le garantizo que lo aplicaremos en la ejecución práctica de las medidas contempladas

la firma que es lo importante muestra el compromiso con los contenidos y valores del pacto las personas firmantes

tienen la máxima representación institucional y esto significa que el máximo compromiso con los contenidos de conciliación de la vida familiar y profesional igualdad y corresponsabilidad eskerrik asko

mire señor urkullu conocemos todos los buenos propósitos del gobierno vasco pero las medidas y los presupuestos son insuficientes esta foto nos demuestra

que le da su gobierno a la igualdad el cero coma once por ciento del total de presupuesto es como la única mujer que aparece en esa foto arrinconada en la esquina es una película protagonizada enteramente por hombres como todas sus fotos

tenemos la foto de este pacto la del acuerdo presupuestario la de los premios korta la foto del concierto económico

federaciones de deporte vascas la foto de los premios gangoiti es sistemático esto parece

y para las mujeres la esquinita los papeles secundarios la foto de la firma del pacto no representa en absoluto

como responsables políticas trabajadoras sociales doctoras enfermeras trabajadoras de residencias trabajadoras de hogar profesoras y por supuesto como madres abuelas amigas etcétera etcétera porque si hablamos de cuidados de sostenibilidad de la vida y de reproducción

ininterrumpidamente esas somos las mujeres la foto de la firma del pacto sin embargo representa una cultura machista

y para nosotras la esquinita nos consta que detrás de estos cinco hombres excluidas del acto de la firma fuera de foco

hay miles de grandes mujeres que son protagonistas de la reproducción de la sociedad de la vida

dejarlas fuera del acto de la firma de un pacto con el que ustedes pretenden intervenir directamente sobre esas esferas de la vida es una falta de respeto a la mitad de la población

con ámbitos tradicionalmente masculinizados pero que aparezcan firmando acuerdos de cuidados y reproducción sin mujeres es el colmo en estos días en este parlamento estamos participando en una formación para promover la igualdad en esta institución

la formadora de una de las empresas más importantes en temas de igualdad de euskadi hace hincapié en la importancia de las imágenes en las instituciones en los medios y en la publicidad

y también para que nuestras niñas y niños crezcan con referencias en todos los ámbitos y sectores con estas fotos usted y su gobierno invisibiliza las mujeres y nuestras niñas y niños no encuentran referentes femeninos este ocho de marzo

por nosotras por las que estamos hoy aquí recogiendo su testigo y abriendo nuevos caminos

y plantearán nuevos desafíos a la sociedad nos toca celebrar las cosas ganadas pero también reivindicar las perdidas señor lehendakari

que proyectan y además que sean exquisitos en conseguir que el cumplimiento de la ley de igualdad y de todos los compromisos que a bombo y platillos sobre igualdad ustedes anuncian eskerrik asko

en la firma o suscripción de cualquier compromiso de tal magnitud de importancia si los representantes máximos institucionales sociales

y no estuvieran los máximos representantes en la suscripción o firma de esos acuerdos usted criticaría que no estaban presentes los máximos representantes

entiendo su pregunta y lo que quiere expresar pero le aseguro que este pacto supone un gran paso para avanzar en igualdad en conciliación y en corresponsabilidad entre mujeres

y le pido que no se quede con la forma sino que atienda al fondo y le pongo un ejemplo señora arana

secretario general nadie piensa yo desde luego no lo pienso que por ese motivo su partido

el compromiso institucional señora arana se expresa en hechos euskadi fue pionera en mil novecientos ochenta y ocho creando emakunde en dos mil cinco con la primera ley para la igualdad de mujeres y hombres

y esto es lo relevante y es lo que las instituciones estamos haciendo y le voy a dar cuenta de algunas iniciativas adoptadas por el gobierno desde la firma del pacto ese día el dieciocho de enero hechos texto de la ley de empleo público que apuesta por la conciliación de vida personal y familiar nuevas propuestas de permisos parentales permisos de cuidado de hija o hijo menor de doce meses permisos

ayudas para atender a las mujeres víctimas de la violencia machista en el seno de la pareja teléfono gratuito y anónimo de atención a mujeres víctimas de violencia de género plan normativo que incluye la elaboración este año de la norma para la erradicación de la violencia contra las mujeres

presentación del cuarto plan vasco de inclusión con actuaciones para favorecer la igualdad de oportunidades o implementar la tasa de ocupación de las mujeres avanzar es una prioridad de nuestro gobierno de hecho la igualdad es uno de los quince objetivos de país que hemos comprometido emakumeok eta gizonok egin behar dugu berdin berdin berdintasunaren alde

gracias presidenta lehendakari consejeras consejeros señorías

el programa de gobierno para esta legislatura en lo que corresponde al departamento de turismo comercio y consumo que usted lidera plantea como iniciativa fomentar la competitividad del sector comercial vasco

plantea impulsar la incorporación del sector comercial a las tecnologías de la información y aumentar los recursos destinados a la adaptación del sector a los nuevos tipos de consumo y compra plantea también favorecer programas de modernización y formación en calidad tecnología y buenas prácticas en el sector comercial usted señalaba hace un año

que necesitábamos ayudar a las empresas que forman parte del tejido comercial a tener mayor presencia en la red y a partir de ahí a tener mayor presencia en el mundo

medios de pago electrónicos etcétera para ello también consideraba necesario

que hagan crecer al sector en este sentido desde el grupo socialista hemos seguido con atención las políticas desarrolladas en este primer ejercicio de la actual legislatura por su departamento con el fin de dotar al comercio vasco de las herramientas necesarias para afrontar los nuevos retos desafíos por cierto a los que ya se enfrenta en un mercado globalizado

en la memoria presupuestaria para el año dos mil diecisiete señalaba su departamento

interior debe ser el fomento de la competitividad y de la modernización aspectos fundamentales para consolidar y crecer al menos en el sector así como de la dinamización de su empleo los socialista apoyamos los presupuestos en los que se articulaban programas con el fin de facilitar el acceso del sector comercial vasco

somos conocedores de que esos programas tenían como objetivo la incorporación gradual de los comerciantes a las nuevas tecnologías y proponían además itinerarios diseñados

con servicios individualizados y atención postimplantación una vez que esos programas se han consolidado consideramos necesario hacer una valoración de sus resultados

y sobre las posibles acciones de mejora y de crecimiento para las próximas convocatorias por eso le preguntamos señor consejero qué resultados ha propiciado en el tejido comercial vasco

en el sector comercial ya no cabe hablar de nuevas tecnologías la red y el impacto transversal que ha provocado en diferentes aspectos de la vida

una realidad cotidiana el sector afronta con diferentes estrategias el reto de desarrollar nuevos canales de distribución nuevas formas de comunicación y de relación tanto con sus clientes como con sus proveedores por tanto

de manera casi obligada una presencia que debe responder a criterios de posicionamiento de producto grado de exclusividad o experiencia de compra

proporciona un plus de competitividad necesario para incorporarse a los nuevos retos por ello creo que es una obligación de todas las administraciones públicas impulsar

políticas que sitúen al sector en posición de poder participar en un mercado cada vez más global y competitivo en este sentido durante este pasado ejercicio dos mil diecisiete en efecto

de nuestras empresas comerciales un servicio de desarrollo de su posicionamiento

un diagnóstico previo individualizado de nuestros técnicos ha ofrecido soluciones a medida dependiendo del grado de implantación y de conocimiento e commerce de cada empresa solicitante en base

en primer lugar a los comercios que no disponían antes de acceder a este programa de ningún tipo de solución de comercio electrónico en marcha pero querían explorar sus posibilidades se les ha dotado con un programa de implantación de un site de comercio electrónico vasco

les hemos proporcionado técnicas y herramientas de optimización y mejora de sus plataformas por último a aquellos negocios aventajados con experiencia avanzada

la vía de la comercialización con cada vez más impacto de las redes sociales con el objetivo

por otro se ha proporcionado a aquellos comercios interesados técnicas de venta

adecuado para la venta en plataformas web agregadoras de ofertas a partir del programa eus commerce se han realizado un total de cuatrocientos cincuenta y seis intervenciones con trescientos noventa empresas validadas

y ochenta en álava el programa ha incluido hasta un total de cincuenta y siete municipios

sino también socioeconómicas el programa ha tenido una valoración positiva por parte del sector que se apoya en dos elementos fundamentales en primer lugar el impulso al comercio minorista y en segundo lugar el desarrollo y asesoramiento profesional

debemos seguir sin duda en la senda de la consolidación digital del sector y de su posicionamiento en el mundo

junto a este programa el departamento también ha colaborado con otros programas para la mejora de la digitalización del comercio vasco

de que debemos seguir impulsando la digitalización del comercio en base a dos ejes la colaboración con el sector y la optimización de los recursos aprovechando las sinergias que puedan producirse por la implementación de diferentes programas la adecuación de procesos tanto de gestión como de administración

una prioridad para nuestras empresas y con ese objetivo vamos a seguir trabajando durante este año también muchas gracias eskerrik asko

señorías le pregunto hoy por los trabajadores autónomos del país vasco según los datos del ministerio de empleo entre el dos mil siete

antes de la crisis ahora en el tiempo en que estamos de recuperación

autónomos lo que es un descenso del seis coma treinta y tres por ciento en ese tiempo en españa también se perdieron muchos autónomos pero en la recuperación hemos podido

incrementándolo y al final en este periodo en españa en el conjunto del país se ha incrementado un uno coma cincuenta y cuatro por ciento antes de la crisis los autónomos dentro del empleo en el país vasco representaban el nueve coma cinco por ciento

por tanto capacidad de emprendimiento capacidad de iniciativa y no hemos sido capaces todavía

en algunos sectores los datos son de preocupar particularmente en el sector del comercio porque en euskadi es donde más ha caído el trabajo autónomo

autónomos lo que viene siendo un descenso del veintiuno por ciento qué pasa en euskadi durante este tiempo hemos tenido planes han desarrollado ustedes estrategias de empleo

o los datos no están ahí la pregunta es qué podemos hacer hacia el futuro para que euskadi realmente sea vista como lo que ha sido siempre una tierra de gente que emprende y un lugar donde aquellos que asumen el riesgo

sienten realmente un apoyo yo le pregunto cómo observa esta realidad cree que los planes que ha puesto en marcha es razonable que puedan prosperar y qué nuevas medidas quiere usted adoptar en ese sentido

en todo caso le diré que el apoyo al emprendimiento y a las personas autónomas es una constante de este gobierno y de las instituciones vascas

el respaldo de su partido a estas políticas se lo reconozco cerramos el año dos mil diecisiete y esto me interesa subrayarlo que cerramos el año pasado el año dos mil diecisiete con un total de ciento setenta y tres mil personas

por lo tanto esta es una cifra que es ya solo un diez por ciento inferior al máximo histórico que alcanzamos en el año dos mil ocho ya solo un diez por ciento inferior al máximo histórico antes del periodo de la crisis y esto no tiene por qué ser un problema cabe recordar que los países con mayor nivel de renta y con un tejido

y económico más competitivo y con mayor capacidad de generar empleo por cuenta ajena son los que tienen menos personas autónomas

muy matizadas es lógico por lo tanto que en una economía con empresas industriales como es la economía productiva vasca

descienda el número de personas autónomas de hecho este mes de febrero pasado ha sido positivo y se ha cerrado

y esto es lo que está ocurriendo en euskadi y en esta senda tenemos que seguir en general eskerrik asko

esto era para que usted se luciera aquí dijera que anunciara nuevos planes por ejemplo puede hacer como han hecho en madrid

creo que se pueden copiar buenas prácticas para animar a la gente

pienso y yo creo también mi grupo presentará una batida de medidas al gobierno para ayudarle pero nosotros no vamos a gobernar ustedes son los que tienen capacidad de verlo yo de usted

un discurso a favor de un ecosistema que

a tomar iniciativa pero me dice usted que el

más bajo de autónomos es índice de la robustez solidez y madurez de nuestra economía o sea es bueno que haya menos

yo creo que no es bueno sinceramente se lo digo no es bueno que en dos mil siete éramos una economía peor que ahora teníamos menos industria que ahora no teníamos menos industria

seguramente lo que está detrás de que en euskadi haya menos capacidad de generar autónomos es que tenemos un problema demográfico claro tenemos un problema demográfico pero tenemos un problema de mentalidad fíjese salen tres mil plazas para osakidetza se presentan sesenta mil personas y la gente está en esa mentalidad

y vivimos también en ese discurso por parte del gobierno paternalismo control tranquilidad cambie el discurso y cambie el discurso para que euskadi sea un lugar abierto

y donde entonces no estemos abocados a que los jóvenes vascos preparados que quieren emprender se van a emprender a otro sitio y van a montar su negocio a madrid y usted tiene que darse cuenta de esa realidad y cambiar el discurso y olvidarse del papel que le hace para decirle todo va muy bien es un dato norma no pasa nada porque

el lugar donde más apetezca desarrollar el talento de toda españa eskerrik asko alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor alonso mi pretensión cuando salgo a la tribuna no

no es intentar no mezclar las cosas e intentar decir la verdad

es una tarea constante el pasado año aprobamos el plan interinstitucional de emprendimiento dos mil veinte

centenar de agentes estamos implicados en este plan para apoyar de forma conjunta y coordinada a las personas emprendedoras

refleja que euskadi está a la cabeza de las comunidades autónomas en indicadores como financiación acceso a las infraestructuras y políticas gubernamentales de apoyo a las personas emprendedoras

señor alonso de acuerdo en el diagnóstico tenemos que seguir proponiendo medidas que faciliten la creación de nuevas empresas y en este sentido esperamos que las mejoras fiscales y en la seguridad social de las personas autónomas planteadas en la ley de reforma de trabajo autónomo aprobada el año pasado

que se animen a crear su propia empresa compartimos el objetivo de apoyo al emprendimiento

iniciativas que hemos propuesto sobre la mesa compartimos el objetivo

de la cultura del emprendimiento reconocimiento social de la persona autónoma apoyo a las nuevas iniciativas empresariales

intraemprendimiento en el seno de la empresa y en general desarrollo de un ecosistema

de nuevas personas emprendedoras esta es nuestra ocupación y compromiso diario un compromiso que es permanente y compartido con el conjunto de instituciones públicas y también con los agentes socioeconómicos señor alonso eskerrik asko

egun on eskerrik asko presidente andrea debo reconocer que mi interpelación de hoy recoge dos de las preguntas que acabamos de escuchar

la igualdad ponemos encima de la mesa y la otra las nuevas emprendedoras en este caso emprendedoras bueno pues me alegro porque lo voy a poner todo encima de la mesa egun on guztioi

hori nire asmoa poneros encima de la mesa y poner el debate encima de la mesa

sino que se le debemos al propio sector como políticos y políticas que estamos hoy en esta cámara

pero porque somos privilegiadas en estar aquí somos privilegiadas pero es nuestra obligación dar respuestas y es a lo que vengo hoy a pedir respuestas

y a las necesidades que no solo salen de las mujeres sino también del sector primario

en los últimos diez años las personas que trabajan en el sector primario se ha reducido a la mitad

y del treinta y siete por ciento de las mujeres relacionadas laboralmente con este sector la mitad

porque son personas sin contrato sin sueldo sin reconocimiento ni a efectos legales y además no cotizan en la seguridad social creo que es la peor figura que nos podemos

una situación absolutamente miserable una situación de dependencia de las subvenciones

a merced de quiénes mandan de unos políticos que no se sabe muy bien tampoco dónde están

por esta situación ya de por sí decepcionante urgen medidas

urgen medidas para hacer una discriminación positiva a las mujeres porque es la única garantía

los pueblos se mantengan vivos las herramientas las tenemos las herramientas las poníamos encima de la mesa quince de octubre del año dos mil quince

era una mujer más de gure soroa era una mujer agricultora más pero aquel día dejé

a petición de la comisión de mujeres rurales junto con tere guerra de gauna una mujer agricultora también y vinimos a hacer una rueda de prensa con la señora tapia porque en aquel día porque en aquellos días confiábamos en que el estatuto de las mujeres agricultoras era una herramienta y era una herramienta válida vinimos e hicimos la rueda de prensa también hubo oposición a aquella rueda de prensa

tenia lagunas entendíamos que podía ser una herramienta para dar pasos

en el dos mil quince había esperanza había

en el dos mil dieciocho puedo decir que es un fraude es un fraude ha sido un fraude y estoy absolutamente decepcionada es más en esa sala de ahí a la derecha salió el señor urkullu nos dio dos besos y nos dijo tenéis una ley de mujeres agricultoras esta os puede solucionar esto puede garantizar

a dinamizarse que las mujeres van a trabajar en igualdad de condiciones fue un fraude fue un fraude y lo viví en primera persona y hoy dos años y medio después casi tres tengo que venir aquí a pedir que se ponga en marcha solamente estamos pidiendo que se desarrolle una ley

como he dicho al principio de hacerlo como apuesta política

dos frases que me han impresionado y me han sorprendido por un lado ha dicho máximo compromiso con la igualdad y la corresponsabilidad

en el sector primario pero también he escuchado que hay un cero coma once por ciento de presupuesto para la igualdad

peso específico tan bajo que tiene lo tenemos muy difícil ha dicho otra también que no se va a quedar con la forma se lo ha dicho a mi compañera eukene arana que vaya al fondo pues eso mismo le pido yo a usted señor urkullu veintidos de septiembre del año dos mil quince justo aquel día

decía un proyecto innovador una palabra impresionante que hace justicia al papel de la mujer en el sector y avanza un paso más en la sociedad comprometida con la igualdad de oportunidades

lo de hablar de innovación se me queda corto porque creo que no es cierto lo siento me van a perdonar dos años y medio más tarde no se ha movido nada ni se ha cumplido ni se han puesto las medidas para poner en marcha ni se ha desarrollado ni se ha ejecutado y no se ha puesto ni un euro

voluntad política así que nos toca como oposición trasladar al gobierno nuestro enfado nuestro rechazo nuestro hartazgo y como persona a mí

incluso dar una explicación porque no se ha hecho nada desde entonces así que sí

en el año dos mil dieciocho se actualiza el informe ostras necesitamos dos años para hacer un informe que

sepan lo que pone en el informe que las mujeres están en desigualdad de condiciones y el año dos mil diecisiete lo usamos para actualizar el informe cuando es un informe lleno de datos del eustat y es un informe tan sencillo un informe que sinceramente no da novedades que cualquier mujer labradora ganadera no sepa

el tres por ciento de las mujeres titulares de las explotaciones tienen menos de treinta y cinco años

de más de sesenta años son las propietarias de las explotaciones creo que es un dato que asusta acabamos de oír emprendimiento

no vale decir que la mesa se ha creado porque es cierto se ha creado justo el veintitrés de enero del año dos mil dieciocho no vale decir que hay un grupo que sí que va a hacer que va a dar pasos creemos que este departamento anda tarde anda muy tarde y que se está perdiendo el tiempo no es una apuesta seria decía que si no han puesto dinero encima de la mesa no es una apuesta seria

y voy a poner el foco en la comisión de mujeres rurales otra crítica más la comisión de mujeres rurales como estructura y como herramienta es efectiva claro participan las administraciones claro

faltan también sindicatos faltan también asociaciones pero el objetivo único de la comisión de mujeres rurales

ha sido organizar el día quince de octubre de todos los años el día internacional de las mujeres rurales yo soy rural pero yo soy trabajadora entonces con que todo un departamento de la fundación hazi en este caso el gobierno se dedique a organizar el día quince de octubre me parece bastante triste me parece

una comisión que no tiene objetivos una comisión que no tiene una planificación concreta que no tienen un planning y que no cuenta con todos los actores entonces falta algo

y realmente estoy preocupada porque en todas estas preguntas no se responde nada voy a ir a la última que es la que más impresiona y me dice

marca dice la marca la ley ya claro la marca la ley

no se pone en marcha así que bukatzeko señora tapia voy a ser muy concreta déjenos hoy una primicia

dígame que tiene un plan que tiene algo cerrado y que tienen un planning dígame que lo va a hacer quién

dígame que se están tomando medidas dígame que ya han hablado con los agentes afectados por favor es que si no no vamos a ningún sitio sindicatos cooperativas organizaciones que les afecta la ley de primera mano porque cualquier artículo que leeríamos estarían

no nos diga que siguen impulsando que siguen trabajando que siguen favoreciendo porque decir eso

es no decir nada es no ir a ningún sitio así que comprométase por favor en plazos en acciones y en euros eskerrik asko

nahiko potentea izan da une honetan badaukagu hori a partir de ahí qué hemos hecho lo podíamos haber hecho en un año es posible

trabajar muy de la mano de todas esas personas que quizás no estaban tan concienciadas como usted misma como muchas de las que están aquí presentes

de todas aquellas que no eran tan visibles y hacer que el ámbito público también estuviera ahí analizado dicho esto

cierto a lo largo de dos mil siete se ha finalizado qué hemos hecho a partir de

que decía la ley y se puso en marcha la comisión de seguimiento de ese estatuto como usted dice con fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho después

qué hemos hecho a qué nos hemos dedicado o qué hemos acordado no podemos dar la espalda que

además del gobierno vasco las diputaciones forales los sindicatos y muchos otros agentes

concernidos por esta ley y por tanto hay que trabajar porque estén presentes en todas las actuaciones que se vayan a realizar en qué líneas de trabajo ha acordado

ponerse en marcha bueno pues esa comisión ha decidido que va a trabajar en el titularidad

en potenciar la representación de las mujeres en entidades del sector agrario en adecuar las normativas en reconocer y visibilizar a las mujeres y su papel en el sector

de género esas son las áreas que ha acordado la comisión de seguimiento que va a trabajar y se ha planteado como primera medida la primera que ya se ha puesto en marcha

en la tercera modificación incluyendo ponderaciones de acción positiva para las mujeres

las negociaciones para su aceptación por parte de bruselas y este trabajo continuará en estos meses hasta que sea finalizado por tanto la primera actuación rápida en cuanto a normativa ya está en funcionamiento

en las cuatro áreas en el primero de ellos el grupo de registro de explotaciones bueno

evaluar la titularidad compartida y cómo tenemos que trabajar todas las instituciones que estamos implicados en el registro

la comisión de mujeres rurales que usted dice que no hace nada pues algo suele trabajar y la persona representante de la dirección de agricultura y ganadería estará también presente el segundo grupo es el de visibilización del propio estatuto evidentemente la acción más importante va a ser la de garantizar la presencia

con diferentes campañas y también en este grupo estarán presentes todos los anteriores personas representantes de eudel sindicatos y demás en el grupo de formación que es el tercero de ellos además de evaluar las necesidades formativas se va a formar no solo a las personas que van a estar trabajando

en las diferentes explotaciones agrarias sino formaremos a personas formadoras que continúen en ese trabajo

la local con perspectiva de género y que se ajuste al marco jurídico existente el pasado veintitrés de febrero

tenemos que trabajar más rápido ya se empieza a trabajar en el grupo de de explotaciones haciendo que el registro de explotaciones que pueda tener el gobierno con las diputaciones forales bueno pues se lleve de una forma coordinada

definido estamos comprometidos a dar los pasos necesarios para que se lleguen a acuerdos entre distintas autoridades competentes y que

adecuada además el grupo de trabajo de visibilización del estatuto y el de formación están ya convocados para el mes de marzo con todas las personas preparadas el grupo jurídico no se ha convocado se va a convocar en abril porque previamente también hemos adquirido el compromiso

un análisis de la normativa que existe en estos momentos cómo la tenemos que tramitar

y las posibles medidas para mejorarlo con ese trabajo realizado previamente

y a partir de ahí definiremos exactamente cuáles son las actuaciones en cada uno de esos grupos definiremos el presupuesto necesario para que puedan ser llevadas a cabo y en caso de que quieran recursos especiales más allá de los que ya están definidos dentro del ámbito

se pondrán y se dispondrán los recursos necesarios para que puedan ser una realidad beraz

me encanta oírle pero hace dos años y medio también me encantó oírle di la cara

pero hay que justificarse entonces sí todos esos pasos están genial

hacen una labor técnica de la leche pero el objetivo de la comisión de mujeres rurales está sin definir define organizar el quince de octubre de todos los años llevar a doscientos o trescientos mujeres ahí organizar ese día y hacerlo más bien

entonces eso sí que me duele porque capacidad tiene herramienta es buena contemos con todos los agentes y pongámosla en marcha

me alegro de estar en la misma línea pero no soy yo sola o sea parece que

hay un montón de mujeres de una asociación pero hay un montón de mujeres

por la cara entonces sinceramente pues

vamos a pedirles a las mujeres que ya tienen bastante lo que puedan dar

para venir hoy aquí estoy segura que alguna ha tenido que dejar todo patas arriba segurísima entonces bueno en el tema del pdr lo seguiremos de cerca me encanta oírlo pero lo seguiremos de cerca el pdr como herramienta fundamental para salvar este sector primario y para salvar los pueblos vivos de momento poco movimiento veremos y voy a ir acabando

puede ser mucha réplica pero la tengo escrita porque no quería que se me olvidase

y es algo tan sencillo como una solidaridad entre mujeres en el contexto patriarcal que vivimos

y el apoyo para lograr el poderío genérico de todas y el empoderamiento vital de cada mujer en el sector primario en el agro

dicho de otra manera necesitamos alianzas necesitamos romper las barreras que nos ponen encima de la mesa que las tenemos a todas horas

y las tenemos que romper día a día así que

con mucho orgullo por cierto somos trabajadoras así que el quince de octubre seguiremos yendo a celebrar el día de la mujer rural pero el día ocho de marzo vamos a celebrar y vamos a celebrarlo cómo así que me dirijo al banquillo concretamente del partido nacionalista vasco porque

ocho de marzo va a ser un día histórico va a ser un día que se van a dar pasos y me da pena que se lo pierdan porque esta reivindicación están encima de la mesa así que yo como mujer rural agraria y trabajadora celebraré y haré huelga el día ocho de marzo eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea bueno en ningún caso he pretendido decir que solamente usted sigue esto y que es una reivindicación suya para nada

un elemento realmente relevante para todas las mujeres que trabajan en el ámbito rural y mujeres rurales igual somos muchas porque vivimos muchas en el ámbito rural igual hay excesivas en esta cámara a juicio de alguien evidentemente no le voy a pedir ni un cheque en blanco ni nada por el estilo

a final del año y vamos a evaluarlo de forma conjunta si ha cumplido las expectativas si nos hemos quedado cortos o si todavía tenemos que trabajar mucho más

además donde están todas las administraciones creo que tenemos que seguirlo muy de cerca como decía usted y nosotros

a cabo y desde luego en el sector primario se están dando muchos pasos y permítame que le dé un ejemplo de lo que ocurrió ayer a la tarde porque creo que viene

usted misma decía al principio que es el emprendimiento la empresa el ámbito rural y la mujer y ayer en gipuzkoa en donostia el premio a la mujer empresaria y directiva

fue para una persona que tiene una explotación agraria muy importante que se dedica además alimentaria y creo que fue la primera y única vez que se ha dado un premio a una empresaria en el sector primario

de esas características de esas características es la primera vez que

se suele focalizar precisamente se puso el foco en una persona que viniendo del sector rural también lo entiende como una actividad económica como una actividad que realmente ejerce de empresa y de tracción y quiero reconocérselo se lo reconocí ayer y creo que hoy es un día muy interesante puesto que estatuto de mujer agricultora mujer

todo en uno se lo dimos ayer ese es el camino que creo que muchas de las que estáis aquí hacéis todos los días pero bueno ella es un ejemplo que ayer lo pusimos en valor eskerrik asko

señora presidenta bien la cronología de lo que hoy le vengo a preguntar de la línea cuatro del metro es una cronología

en el año dos mil ocho deciden ustedes abandonar decide el gobierno vasco abandonar el hacer un tranvía para llegar al barrio bilbaíno de rekalde y apostar por

y así en el año dos mil nueve se pone de manifiesto que se va a empezar a estudiar esta línea

el señor gasco afirmó que las obras podrían comenzar a finales del año dos mil doce

el señor arriola que entonces era consejero de vivienda obras públicas y transporte anunció su apertura para el año dos mil dieciséis ese mismo año también en el dos mil nueve

el gobierno vasco anunciaba la posibilidad de ampliar esa línea cuatro desde moyua también hacia matiko con dos paradas intermedias

de rekalde en el año dos mil once se aprueba el anteproyecto de la nueva línea y se pone de manifiesto que la ejecución de la misma duraría cuarenta y siete meses

pero ya a finales del año dos mil catorce

se dice que para este que para el gobierno vasco esta línea de rekalde no es una prioridad

siendo la consejera del ramo señalaba que no había partida en el año dos mil quince pero que ni la iba a haber en el dos mil dieciséis ni en el dos mil diecisiete porque como ella decía había otros proyectos más prioritarios en septiembre del año dos mil quince sin embargo desde la diputación foral de bizkaia y por parte del consejero de transportes el señor reyes

se señala que no que la línea cuatro no se ha parado y que la redacción del proyecto constructivo de esa línea cuatro de metro correspondiente

de ese año pero la verdad es que poca influencia

pero desde luego esta línea de metro poco vemos

seguimos con la cronología en febrero de dos mil diecisiete el año pasado portavoces de su departamento vuelven a reiterar que no es una prioridad para el gobierno vasco

solo se ejecutarían en su caso trámites administrativos relativos a esta línea de metro no es una prioridad aunque esto no es del todo cierto

sí que lo es sí que parece ser una prioridad en campaña los líderes del partido nacionalista vasco y los del partido socialista también hoy socio de este gobierno

de la línea cuatro de la línea cinco como recurso electoral igual que se tira del compromiso

en los procesos electorales en los programas electorales vemos que esta línea sí aparece se lo he dicho en otras ocasiones en el programa electoral del partido nacionalista vasco para la legislatura dos mil doce dos mil dieciséis aparecía esta línea junto con la línea cinco ahora eso sí la legislatura pasada pasó en blanco

también y en el acuerdo de gobierno firmado con el partido socialista también aparece la línea pero luego cuando se trata de pasar del papel cuando se trata de plasmarlo en un compromiso político y económico entonces ya se esfuma entonces queda en un eslogan político

porque este compromiso no se acompaña de una actitud proactiva en favor del transporte público y sostenible

al transporte público y sostenible no es solo decirlo es también llevar a cabo actuaciones que así lo demuestren y acciones que vayan más allá de la planificación y la reflexión

y reflexionando tenemos que pasar a la ejecución de obras e infraestructuras en las que se plasme de verdad esa apuesta por la sostenibilidad porque cuando llega la hora

de impulsar la línea cuatro prometida entonces sí hablamos de disponibilidad presupuestaria de que no tenemos disponibilidades

ahora que nos estamos recuperando qué hay de la línea cuatro

porque lo dije en la otra ocasiones y lo quiero reiterar ahora ustedes cuando se trata de reclamar a eso que llaman madrid

han reclamado la y vasca en épocas

que existieran dificultades económicas la verdad es que no era un impedimento para que ustedes con la misma fruición y la misma pasión reclamasen

reclamación no ha hecho falta porque la apuesta y el compromiso político y económico del gobierno del partido popular con

en todo momento pero si no lo hubiera estado entonces ustedes como le digo hubieran dicho que es que no hay compromiso ni económico ni político si eso lo trasladamos aquí

señora consejera que el gobierno vasco no tiene ningún compromiso ni político ni económico ni con los vecinos de rekalde ni con bilbao

una prioridad y cada vez queda más claro la última vez que interpelé al señor lehendakari que usted me contestó nos lo fió todo

me contestó que la autoridad de la movilidad tenía que analizar

en su conjunto en mayo del año pasado esa autoridad ya anunció la redacción del plan estratégico de transporte público que además de obtener esa fotografía más actual determinase cuál eran las líneas maestras de las instituciones durante la década siguiente los pliegos técnicos de ese plan

dos mil dieciocho dos mil veintiocho se aprobaron en junio entre las líneas que debe fijar el plan está por ejemplo si es

con qué prioridad se dice que se determinará la demanda potencial de estas infraestructuras por hacer su urgencia

y si hay otras opciones incide en que cuando se observa en conjunto el sistema se van otras alternativas como mejor solución a las necesidades y además

yo le pregunto señora consejera de verdad de verdad diez años más tarde vamos a volverlo a analizar diez años perdidos diez años que no han servido para nada porque estamos peor que hace diez años peor que en el punto de partida y ni tan siquiera vamos a volver

se tenía claro la necesidad de una línea cuatro de metro que conectará a los vecinos de esos barrio de bilbao de barrios olvidados como rekalde

de barrios olvidado de bilbao con el centro de bilbao y con

hay que ver si es adecuado la existencia de esa línea cuatro ahora se dice que hay que

la apuesta por la bici qué la van a decir a los vecinos de rekalde que vayan todos en bici esa va a ser su apuesta

pero dos cuestiones le quiero decir a este respecto primero a los vecinos de zumaia durante diez años no creo que se les haya estado prometiendo

del metro han ido ustedes en campaña electoral a zumaia a decir que iban a poner una línea de metro

es que no se trata de gustar no se trata de gustar se trata de que cuál es la mejor opción y ustedes durante todos estos diez años han considerado que la mejor opción la movilidad de los vecinos de ese barrio era tener una línea de metro

desde luego no funciona si el objetivo es quitar los coches de bilbao quitar los coches de las carreteras hay que hacer apuestas de verdad por eso
yo le pregunto cuál es la intención del gobierno vasco con relación a esta línea eskerrik asko llanos andrea

que creo que es relevante y es que siendo consejera

le quiero recordar dos mil cinco dos mil nueve se llegó a adjudicar la obra del tranvía a rekalde

y sin embargo se desistió porque parece que había ciertas dificultades y que no era lo más adecuado luego un compromiso que ya existía con financiación y adjudicado alguien decidió que no lo quería hacer partamos de esa situación a partir de ahí parece que lo ideal es una línea cuatro de metro y el dieciocho

el estudio informativo se empiezan a hacer toda la evaluación de impacto ambiental

dos mil quince dos mil dieciséis hay que adecuar el estudio informativo porque la normativa ambiental se modifica con el consiguiente complementario en cuanto a coste también en octubre de dos mil dieciséis se inicia la redacción ya del proyecto constructivo de obra civil para el tramo matiko moyua

con una previsión de finalización en julio de dos mil dieciocho luego todavía estamos en plazo

de esa redacción de este proyecto constructivo que se está realizando se hace un planteamiento constructivo absolutamente diferente del que existía en el estudio informativo publicado en dos mil doce es decir una solución constructiva con una estación en moyua que se encaverna frente a una que

eso hace que el estudio informativo no sirva para nada y haya que volver a empezar bueno cómo estamos entonces en estos momentos continuamos trabajando el proyecto constructivo de matiko moyua

pero hay que reformular el estudio informativo porque no nos sirve para esta nueva solución hay que terminar el proyecto constructivo moyua rekalde y

no está parada a usted le puede parecer muy sencillo hacer todo esto pero es que

la planificación en un sistema de transporte como es el metro es muy compleja y usted lo sabe perfectamente

qué costes de inversión por cierto en estos momentos

está realizado un previo de lo que puede resultar en coste son trescientos setenta millónes de euros en obra más lo que supondría lo que tiene que suponer

pero es que además de esa línea cuatro no solamente estamos en la línea cuatro estamos evaluando y realizando el estudio informativo y los proyectos constructivos de la línea cinco que también se requieren porque también aparecen en nuestro programa de gobierno línea cuatro y línea cinco

con un coste estimado también de doscientos sesenta y seis millónes de euros pero también se está realizando

de la conexión de la línea tres ya finalizada con el aeropuerto de loiu por tanto también ahí se está realizando todas las previsiones de acuerdo con el programa de gobierno

más de setecientos millónes de euros cada uno se encuentra en una situación diferente pero es que además tenemos que trabajar algo de lo que usted me decía

no es que el gobierno vasco reclame o no solo el gobierno vasco reclama que la y vasca sea finalizada sino que la propia europa y usted lo sabe bien también

pone en grave riesgo las ayudas que se están trayendo desde europa porque es una infraestructura que tenía que estar finalizada para el año dos mil diez y estará con un poco de

creo que estamos trabajando a buen ritmo en este momento y además con la lealtad suficiente como

en ese debate pero no solo lo pide el gobierno vasco es una reclamación europea además se está trabajando por parte del gobierno vasco además de eso la variante sur ferroviaria

que pueda ser un tranvía o pueda ser un autobús eléctrico inteligente utilizando diferentes modos de construcción y hay que trabajarlo con el propio ayuntamiento y en ello se está y además

es decir muchos proyectos que requieren reflexión sí y no se lo niego

cada uno de los proyectos y además finalizada la reflexión y los proyectos constructivos evaluar lo que se denomina coste beneficio que ustedes en tantas ocasiones suelen sacar en diferentes proyectos y evaluar en función de la mejor solución el coste y el beneficio que vamos a obtener y eso es así

de hacer todos estos proyectos no nos podemos olvidar una situación de endeudamiento muy importante que tenemos por parte de diputación y de gobierno que asciende nada menos y nada más que en diciembre de dos mil diecisiete a trescientos setenta y cuatro millónes de euros largos

sí es cierto que la política de inversión en infraestructura la tenemos que hacer planificándola bien realizando el análisis coste beneficio y preparando todos los proyectos para que en el momento necesario puedan llevarse a cabo y no tengamos que empezar a realizarlos pero es cierto la situación de la capacidad de inversión del gobierno vasco hoy la de hace unos años y por mucho que este mejorando la recaudación usted sabe que además tenemos otros elementos que tenemos que ir amortizando la deuda y además que nuestra capacidad de endeudamiento es

hacer realidad aquellos proyectos que sean

con la máxima capacidad y en alguna ocasión habrá que ver si es una línea de metro una de tranvía o un autobús la mejor solución

toda la planificación necesaria para que sea una realidad y una vez finalizada la planificación y realizado el análisis coste beneficio

se tomará la decisión oportuna y se decidirá si primero hay que poner en funcionamiento la línea a la universidad hacia leioa si hay que hacer la línea cuatro

actuación se tomará la decisión entre todas las instituciones implicadas con todos los proyectos finalizados y con toda la seriedad y el rigor del mundo como no me cabe duda

porque le da la ocasión de salir aquí

publirreportaje de lo que aparece en el porque luego si se baja a la realidad de las obras se queda en eso señora consejera en publirreportaje

virtud que es que nos hace una faena que dice de todo en la intervención y que lo mismo le vale o le quiere valer

que de verdad se compromete con la línea de rekalde porque me dice que es que hay que volver a hacer el estudio informativo y por eso no se puede adjudicar el proyecto constructivo del tramo moyua rekalde lo mismo le vale para eso

para que no se va a hacer la línea de metro cuatro y cinco ni el tranvía

porque es que me hace el publirreportaje inicial y luego ya después

de forma muy sibilina y empieza a hacer las matizaciones como también ha intentado de forma sibilina echarle la culpa al gobierno del partido socialista del señor patxi lópez que existía ya una pero que luego se decidió no seguir con ella mire ustedes llevan desde la legislatura pasada

es que están por lo menos con relación a la línea cuatro y línea cinco encallados totalmente todo su publirreportaje que aquí

es eso y usted me habla de lo de la y vasca y me imagino que cuando

pero cuando ustedes tienen la encomienda de la obra es porque son incapaces

afrontar todas las infraestructuras propias del gobierno vasco más estas encomiendas digo yo y me habla

cuál es la diferencia gobierno central compromiso con euskadi gobierno vasco cero

con rekalde cero porque claro usted me habla de

que llevamos años que es que esto no ha surgido en la legislatura pasada que llevamos tiempo con esto y yo le aseguro que si fuera una prioridad hubieran puesto el acelerador

pero no es que no es una prioridad porque luego ustedes

me saca lo de que claro que es que hay que reflexionar entonces hay que ver cuál es la solución más óptima si es entre metro pues dígalo claramente yo

línea cuatro el resto ya hablaremos en otras ocasiones

sí o no es bien sencillo sí o no porque el resto lo que usted

de la movilidad en bizkaia es que el resto sabe lo que es una patada hacia adelante

cuando no quieres tomar una decisión crea una comisión pues esto es lo mismo cuando no quieres un compromiso

ponte a reflexionar y yo desde luego el gobierno vasco

no se les puede achacar porque reflexionar reflexionan vamos que si reflexionan pero a todas horas

pero es que a los vecinos de rekalde a los vecinos

la reflexión el planteamiento no les sirve lo que quieren es compromiso lo que quieren es que se les diga si el metro sí o no y es más ya ni tan siquiera

en este momento se conforman con que sea una realidad el proyecto constructivo del tramo moyua rekalde

yo sí y se conforman con eso fíjese si son

a esta cámara a ver qué dice el resto de los grupos ahora

señora llanos pues si usted intuye que a mí me encanta y se dedica a hacerme

pero lo que sí veo es que no sé creo que no me ha escuchado más que lo que le ha interesado

julio de dos mil dieciocho pero es que el proyecto constructivo tiene un tiempo y el estudio informativo tiene un tiempo y no me diga que adjudique el proyecto constructivo no está adjudicado desde hace tiempo lo que se está haciendo es ejecutándose

exactamente igual además con la revisión del estudio informativo pero es que me escucha lo que le digo o no porque claro parece que lo tengo que estar repitiendo el proyecto constructivo está ahí y se va a realizar y se va a revisar el estudio informativo en la medida que

pero claro a partir de ahí como no somos la única administración concernida habrá que trabajarlo dentro de y

la autoridad de la movilidad de bizkaia donde todas las instituciones competentes y con intereses tendrán que trabajar y tendrán que analizar cuáles son las prioridades para el territorio de bizkaia y lo tendrán que analizar entre todas lo tendremos que analizar entre todos y lo de compromiso cero con bizkaia no me haga reír por favor porque toda la cámara se debe estar desternillando de risa bueno a qué estamos jugando se lee usted los documentos se lee

o simplemente pone líneas blancas encima de las partidas correspondientes porque es que es un argumento que en fin que se cae por su propio peso no merece ni que se lo conteste de verdad cuando hablaba

y vasca no estaba hablando de la encomienda no yo le he hablado de la entrada en capitales y cuando hablamos de la entrada en capitales en las tres capitales en dos de ellas soterradas implica que el gobierno tiene que poner recursos propios no es encomienda de gestión y usted lo sabe y si no lo sabe estúdiese

y en ese caso implica recursos propios de la administración

va sobre recursos propios de la administración luego implicación de gobierno vasco poca no no es cierto y usted lo sabe pero si sigue haciendo demagogia pues vendré como usted dice

yo la parte de verdad que usted no ha querido escuchar entiendo que uno cuando viene aquí

el consejero o consejera se suele saber sus presupuestos y las actuaciones que tiene que llevar a cabo y en ese sentido por favor vamos a intentar trabajar para que las cosas se hagan de la mejor manera posible en bizkaia y en cualquiera de los otros dos territorios respondiendo a las necesidades que hay con la mejor de las soluciones en cada caso

apriorismos no vamos a hacer el trabajo correspondiente vamos a hacer el trabajo de estudios informativos proyectos constructivos cuál es el coste de cada una de esas obras el beneficio que se va a obtener y cuál es la mejor solución y a partir de ahora va a ser nuestra forma de actuar ya se está realizando así y desde luego no nos vamos a de ese tren y permítame la expresión en ese sentido pero también desde las autoridades de movilidad en cualquiera de los tres territorios nuestro compromiso es ese eskerrik asko

une honetan gaude egoera honetan por tanto señalar que apc venía de una situación de un concurso de acreedores

conseguido levantar ese concurso pero que en caso de que no exista una buena solución saben los firmantes del convenio que automáticamente la empresa en segunda instancia no es que vuelva a solicitar concurso de acreedores sino que va directamente a liquidación

en este momento y por tanto nos encontramos en la situación que usted

ante esta situación en las diversas reuniones que se han mantenido por parte del departamento con los trabajadores se les han transmitido tres mensajes muy concretos en la línea de lo que nosotros estamos haciendo el gobierno va a colaborar y colabora en la búsqueda de inversores como siempre que puedan estar interesados plantear una oferta en el marco del procedimiento de liquidación en el que nos encontramos que puede dar continuidad a todo o a la mayor parte del trabajo o la actividad de

en las relaciones laborales siempre y cuando las partes lo pidan es condición sine qua non pero en este caso

que no es un primer concurso de acreedores sino que en esta situación de liquidación no se da esta circunstancia pero continuamos trabajando

de trabajo y en tercer lugar también les hemos

la mejor de las situaciones en este momento no es la de encontrarse

absolutamente respetuosos con las decisiones que tomen en ese sentido
continuamos dando los pasos necesarios para que la continuidad de esta empresa en la medida de nuestras posibilidades se vea garantizada eskerrik asko eskerrik asko

el gobierno se compromete a ceder de manera inmediata a las instituciones vascas los terrenos que actualmente ocupa la central de lemoiz etcétera

haztegi proiektu bat dagoela esanez y a basordas pues también parece que quiere llegar un cable submarino desde burdeos y entre

con aquello que sin lemoniz íbamos a comer berzas alumbradas con velas

tantos años después van a llegar a lemoniz electricidad de origen nuclear y langostinos de piscifactoría en el último pleno usted

yo le recojo el guante y aquí mando mi primera recomendación gratis y para los de casa y dejo para el señor retortillo un apunte un eslogan para la campaña de turismo que viene ni berzas ni velas langostinos nucleares a ver si cuela

eta iberdrolarekin egiten ari den edo ez queremos saber también si el proyecto de la piscifactoría que se ha presentado tiene realmente fundamento o va un poco de globo sonda queremos saber qué va a pasar con todo el espacio afectado las doscientos ocho hectáreas

queremos saber y los habitantes de lemoiz quieren saber si van a tener capacidad de decisión o van a ser convidados de piedra en la toma de decisiones

y por supuesto también queremos saber cómo va a compensar iberdrola la ocupación forzosa de todo este terreno durante estos cuarenta años por eso preguntamos si las cosas se están haciendo bien porque

señor otero además de nombrarle asesor mundial creo que le voy a nombrar amigo del clúster del papel porque suele venir aquí con muchos dibujos en papel y bueno

pero bueno bromas aparte aipatzen zenuen

dirección general de sostenibilidad de costa y mar también está involucrada puesto que hay una parte que está en el mar y es dominio público

y la dirección general de energía y minas del departamento de desarrollo económico e infraestructuras del gobierno vasco que es quien en definitiva

se ha aclarado cuál es el procedimiento adecuado para que eso sea una realidad que nos ha costado bastante más de lo que usted puede pensar

se está procediendo a realizar la desafectación de los terrenos

puesto que es una parte importante para después proceder a recuperar la concesión

exaktamente zure eremua baino pts ba dago pts bat dago se plantean dos alternativas en la intervención en la cala basordas

implantación de actividades compatibles con la protección del litoral priorizando aquellas que coadyuven a la recuperación del emplazamiento y en ambos caso se precisará de la redacción de un plan especial de ordenación el pts dice que el organismo ejecutar ayuntamiento de lemoiz iberdrola diputación gobierno vasco dirección general de costas y no sé si se ha hecho esto o sea yo tengo un poco de miedo de que se esté poniendo esa frase que

o sea digo que hemos vendido un proyecto como muy adelantado y todavía entiendo que no hay este plan especial de ordenación

por abusos sexuales nos muestran que todavía hoy niños niñas y adolescentes enfrentan numerosos miedos y obstáculos para comunicar y denunciar que están sufriendo

en junio del diecisiete se llegó a un segundo acuerdo en esta legislatura sobre esta materia y pasado un tiempo queremos volver a poner el foco en la prevención de la violencia sobre la infancia y saber

en relación al primer punto del acuerdo que se refiere su pregunta comentarle que desde el departamento de empleo y políticas sociales trabajamos para dar un especial impulso a los observatorios del ámbito de los servicios sociales que suponen una herramienta fundamental para la definición de las políticas sociales queremos que los distintos observatorios tengan coherencia y estén coordinados ya que de esta forma toda la información que nos aporten la harán desde una perspectiva integral y complementaria

para el próximo día diecinueve de marzo en esta reformulación y coordinación

contamos también con la colaboración de la comisión permanente sectorial de atención a la infancia y a la adolescencia allí se ha presentado un nuevo sistema de indicadores más acorde

los informes de situación de la infancia y la adolescencia en euskadi en cuanto al segundo punto del acuerdo al que se refiere su pregunta en los presupuestos del año dos mil dieciocho se ha consignado un importe de cuarenta mil euros para la realización de estudios para el observatorio de la

y entre estos estudios se contempla precisamente la elaboración de un informe de evaluación con recomendaciones sobre las políticas para la prevención detención precoz atención protección y reparación en situaciones de violencia de maltrato abusos sexual explotación sexual pornografía infantil trata

en los ámbitos del hogar la familia del sistema educativo

y sistemas de protección y responsabilidad penal adolescente además también está a disposición de los niños y niñas y adolescentes vascos

liderado por personal profesional y cualificado para atender cualquier inquietud o problema que les afecte a ese respecto además tenemos también en marcha varios proyectos que buscan un apego seguro y está demostrado que fomentar el vínculo entre los progenitores y el bebe los niños pequeños
previene el maltrato infantil en el ámbito familiar mila esker eskerrik asko artozabal andrea guanche andrea zurea da hitza

con la violencia estamos ante una de las formas más graves de vulneración de los derechos de niñas niños y adolescentes y esto nos preocupa y entendemos a la luz de sus palabras que también nos ocupa a todas y a todos la violencia es un terrible factor de vulneración pero sobre todo y recordando las palabras de aitziber bañuelos de eraikiz kolektiboa en este mismo parlamento sobre la violencia sexual sobre la infancia

amaitu behar baitugu porque informar a la familia con niñas y niños que han sufrido abusos es contribuir a romper ese pacto de silencio reconocer a las víctimas

con discursos públicos en torno a estas violencias y medidas reales

que se puede y se debe denunciar porque la ciudadanía y las instituciones vamos a estar a su lado

del conjunto de la sociedad hace ya meses impulsamos esta iniciativa de la que hablábamos para contribuir a mejorar esos mecanismos de protección en este parlamento hemos llegado ya por unanimidad a dos acuerdos sobre el tema y no es ánimo de criticar o de que parezca que no se hace nada pero sí quiero aprovechar este espacio para preguntarle sobre qué fechas se prevé la publicación de esos estudios sabemos que se han hecho y desde luego achacamos gran parte de esos avances a los buenos acuerdos y los compromisos compartidos pero sí que

bastante más invisible de lo que debiera en ese sentido si nos hubiera gustado que su departamento

nuestra y por tanto en este caso vamos a coincidir de forma

le comentaba anteriormente las iniciativas que hemos hecho y lo único que le voy a repetir es en lo que nos hemos centrado en fortalecer ese observatorio de la infancia dotándole de más y mejores contenidos y competencias también estamos trabajando con constituir una mesa técnica para el conocimiento y el análisis de las necesidades de los niños y niñas y adolescentes en euskadi como le he comentado

para el observatorio de infancia y adolescencia que contemple la realización de un informe de evaluación con recomendaciones sobre las políticas de prevención detección precoz atención protección y reparación en situaciones de violencia y cualquier tipo de violencia hacia los niños y niñas y adolescentes

también es necesario dotarnos de herramientas que sirvan para prevenir situaciones de abusos a los menores y herramientas ágiles para la protección de los mismos y en esta cuestión es fundamental la colaboración interinstitucional como ustedes saben gracias a esta colaboración se ha actualizado el decreto que regula el instrumento valora que

de los servicios sociales tanto municipales como forales de atención y protección a la infancia

hemos trabajado para conseguir agilizar los procesos de intervención prevenir atender a los niños que sufren situaciones graves es una cuestión que nos

gracias señora presidenta buenos días de nuevo a todos señor consejero a finales del año pasado se conocía la decisión del gobierno vasco de conceder una vivienda en vitoria concretamente en aztegieta

conocida como los pitxis que habían causado

tenían allí atemorizados a los vecinos con los que no sabían convivir y a los que amenazaban con estos antecedentes es normal que ante la noticia de que se va a conceder una vivienda en aztegieta los vecinos quieran información sobre dicha concesión y que estén preocupados por la misma en este momento desde este grupo no vamos a poner el acento en la decisión del departamento de vivienda ni tampoco en la familia que como digo ha protagonizado

como ponemos de manifiesto en nuestra justificación los vecinos por medio del presidente de la junta administrativa pidieron ser recibidos por su departamento hasta

ha solicitado al departamento que usted dirige una reunión con el fin de ser escuchados

y de exponer sus puntos de vista sobre determinados asuntos y ustedes hasta el día de hoy se han negado a recibirles no entendemos esa cerrazón por parte

con esos vecinos un gobierno que hace gala de ser el gobierno de las personas debiera de empezar por lo primero y fundamental que es escuchar a las personas recibir escuchar reunirse ya sea con una asociación con un colectivo o con una persona a nivel individual no implica darle la razón en sus planteamientos sino que es

por ello ante estos hechos queremos solicitarles que nos conteste a la siguiente pregunta qué criterios justifican que su consejería hasta este momento haya negado

gracias señora presidenta señora llanos nuestro departamento

a todas las personas y entidades y si es posible reunirnos con ellas y en este caso también se ha respondido sobre la cuestión que nos ocupa

mire la primera reunión fue solicitada el día trece de diciembre apenas unos días después de que la vivienda asignada a la familia manzanares cortés

la reunión tenía por objeto y leo textualmente dar una solución a esta realidad

no puedan ser reconducidos cualquier persona entenderá por el texto de la solicitud que la finalidad de la cita no era conocer el mecanismo por el cual se le adjudicó a esta familia la vivienda que alokabide tenía en aztegieta

una revocación de la decisión administrativa que se adoptó de forma ajustada de derecho y siguiendo el procedimiento en respuesta a esta carta

exhaustivamente a los representantes de la junta administrativa qué baremos objetivos y reglados se utilizan y por qué procedimiento se produjo la adjudicación

convino con la presidenta de la asociación de concejos de vitoria gasteiz

y con ella misma el pasado día diecinueve para explicarles todos estos extremos sin embargo a última hora

y condicionar la reunión a que fuera con todos los miembros de la junta

que ellos habían decidido por lo tanto voluntad y diálogo para dar las explicaciones

ha habido y seguirá habiendo ahora bien si lo que se pretende es otra cosa eskerrik asko arriola jauna

señor consejero voluntad de diálogo su departamento ha mostrado más bien poco la reunión ya tenía constancia pero ustedes querían imponer quién iba a ir en esa reunión y ellos no querían en cualquier caso me alegro si de verdad van a celebrar la reunión porque en la primera contestación y me la he dejado ahí textualmente dicen que no

y parece ser que no se van a reunir porque usted ya prejuzga ustedes prejuzgan la intención que tienen los vecinos aunque la intención suya sea esa usted no está obligado

consejero y como político como responsable de un departamento sí está obligado a recibir a los vecinos en la última contestación además ustedes hacen referencia

la familia provoca animadversión como queriendo hacer ver si uno se lee esa contestación

unas personas con prejuicios hacia determinadas familias y yo le quiero decir señor consejero que no es así que lo que están es preocupados pero es que tienen motivos para estar preocupados porque en el año dos mil dieciséis miembros de esa familia estuvieron investigados por veintitrés robos

porque acumulan más de trescientos cincuenta denuncias por amenazas agresiones allanamiento robos

se manifestaron ante la situación que vivían en su barrio con esta familia porque miembros de esta familia han demostrado con creces que

que desde luego precisamente fácil y pacífica con ellos no es la convivencia y por eso es normal que los vecinos estén preocupados y por eso es pedir demasiado

de empatía de sensibilidad para recibir a unos vecinos que están preocupados y que lo único que quieren es ser escuchados
yo creo que no y espero que esa reunión se dé eskerrik asko llanos anderea arriola jauna zurea da hitza

que una comunidad pueda tener reticencias ante la llegada de unos vecinos determinados sobre todo si previamente se les ha presentado y estigmatizado sin mayores pruebas

pero esta no es la cuestión de nuestro departamento nuestro departamento tiene que determinar si esta familia tiene derechos en cuanto a vivienda y objetivamente cumple los requisitos para acceder

y tampoco cuestiono a los vecinos que esta familia tenga derecho a estar en una vivienda de hecho en sus escritos dicen que están de acuerdo con que esta familia disfrute de una vivienda y pueda vivir en paz pero consideran

no es el lugar adecuado para esas personas cuestionan por qué no les ha tocado la vivienda en otros barrios como salburua

la cuestión es que cumpliendo la ley y el procedimiento

punto esta es la respuesta y se ha explicado exhaustivamente los criterios y procedimientos objetivos en base a los cuales se adjudican las viviendas y la cuestión

le voy a decir una cosa yo he sido alcalde en mi vida se me ocurriría condicionar una reunión con el gobierno o con la diputación de gipuzkoa en mi caso a que estuviese presente todo el pleno municipal

en alguna medida a esa junta en la medida que después de todo este proceso se había conseguido con intermediación de la presidenta de las juntas administrativas de vitoria

no sé hasta qué punto tiene sentido que se fracase y no se lleve a cabo esa reunión

pero lógicamente en un contexto y podemos trabajar las cosas y explicar

el nueve de febrero finalizó la campaña de prematrícula para el próximo curso ayer se publicaron las listas provisionales y el próximo veintidós se publicarán las definitivas

para que los centros que tengan más demanda que oferta de plaza puedan pedirlo por ello realizamos la siguiente pregunta

en caso de que en el periodo de baremación la ikastola jakintza solicite la modificación de la planificación escolar

señora consejera ordizia solo es un ejemplo más una localidad más

una realidad que se ha convertido en algo habitual en otros municipios de euskadi nos estamos refiriendo a que la inmensa mayoría de los niños y niñas extranjeros están escolarizados en la escuela pública vasca nos estamos refiriendo

existe y que es una realidad en euskadi y nos estamos refiriendo a que es urgente que este gobierno en general y su departamento en particular adopte medidas que revierta esta situación medidas que garanticen la igualdad

y que contribuyan a fortalecer la escuela pública y no a seguir aumentando la red privada concertada como señalan numerosos estudios es el isec el índice socio económico y cultural de las familias uno de los principales aspectos de la segregación

el consejo escolar de euskadi lo deja claro en su último informe

ha denunciado que el noventa y dos por ciento del alumnado de nacionalidad extranjera de infantil está escolarizado en centros públicos y el ocho por ciento en la red concertada que en diecinueve centros públicos de gasteiz se supera el porcentaje del treinta por ciento

además que en dos ikastolas privadas de esta ciudad financiadas con fondos públicos solo hay dos estudiantes de nacionalidad extranjera

que mientras el porcentaje de alumnado extranjero del colegio público urdaneta ha subido en apenas tres cursos del catorce coma nueve al treinta y seis coma ochenta y dos pasando de tener ochenta y dos alumnos a tener doscientos veintidós doscientos veintidós señora consejera

se ha mantenido en el seis por ciento doscientos veintidós alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo

un alumnado el extranjero con necesidades especiales de apoyo educativo que provoca una huida del alumnado autóctono

lo que supone que la ikastola haya recibido peticiones de matriculación superiores al número de plazas que tiene concertadas y que ello motive la petición de disponer de más plazas nosotros creemos que este solo un ejemplo y nos preocupa que el departamento de educación pueda estar favoreciendo la red concertada porque su gobierno apuesta y apoya la escuela pública verdad porque

supone apostar por una escuela vasca más inclusiva que contribuye a facilitar la cohesión social en los municipios vascos

y ponga en marcha medidas urgentes destinando dinero y recursos

jakintza ikastola recibió resolución provisional con respuesta desestimatoria a su solicitud de aumento de unidades planificadas y decidió presentar alegaciones dentro del plazo establecido

desde mi escaño agradecería a la señora consejera que diera una primera respuesta

y yo tomaría el segundo turno gracias eskerrik asko bengoechea andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

hezkuntza herri erronka da desde una visión integral de la educación compartimos la necesidad de avanzar en la calidad del sistema educativo vasco promoviendo la equidad la cohesión social

así como los derechos humanos y sobre todo la defensa y atención de la diversidad

nuestro compromiso es claro y nuestra apuesta por la inclusividad también bikaintasunerantz deialdiaren barruan

en el primero el proyecto se centra en la formación del profesorado sobre el enriquecimiento curricular las altas capacidades las inteligencias múltiples así como la detección en el centro del alumnado con necesidades diversas en cuanto a procesos de aprendizaje en el segundo año el proyecto se centra en la atención al alumnado y el desarrollo de metodologías activas en el aula que contribuyen al enriquecimiento curricular y el tercer año se enfocará a la consolidación del proyecto y a la evaluación de los resultados según los indicadores establecidos en el proyecto finalizados los tres años del proyecto el centro podrá presentar su experiencia a los demás centros a través de las modalidades partekatuz ikasi como centro tutor

señora consejera no dudamos en absoluto de que tenga usted

algunos datos que creo que son necesarios en euskadi tenemos en los distintos grados trescientos setenta y dos mil ochocientos veintidós alumnos

son alumnos de altas capacidades quedémonos con el dos por ciento

siete mil cuatrocientos alumnos de altas capacidades y usted hace plan pero hace planes que todavía no está detectado porque detectados

datos que nosotros hemos podido obtener es más o menos cuatrocientos alumnos pongamos que estamos equivocados pongamos que es el doble ochocientos seamos todavía más generosos pongamos que son mil pues qué pasa con los otros seis mil cuatrocientos alumnos usted sabe igual que yo que entre los niños

entre el treinta y el cincuenta por ciento presenta fracaso escolar y un setenta por ciento problemas psicológicos entonces conocemos todos sus planes

también quiero decirle una cosa que estamos a dos mil dieciocho y el primer decreto que hay en el gobierno vasco sobre el tema

de hace veinte años usted solo lleva seis pero hace veinte años ya tuvimos un decreto para tratar de la manera correspondiente a los alumnos de alta

y tenemos cuatrocientos detectados por nosotros o sea tenemos detectados cuatrocientos el cero coma uno por ciento otras comunidades españolas tienen ya detectados el uno coma uno por ciento

señora consejera yo siempre le digo que creo que es usted una trabajadora infatigable pero es que ya va siendo hora de exigir resultados y nosotros

lleva usted seis años más o menos siendo consejera

cada vez son peores en el tema este de las altas capacidades como le digo una detección mínima proyectos mucho pero fallamos en altas capacidades fallamos en pisa donde igualdad e isec somos los peores

fallamos en el informe de las mejores universidades del mundo tenemos un fracaso

parte de españa en lengua y literatura castellana no estamos presentes entre la lista que ha salido de las mejores universidades por materias señora consejera créame que a mí no me gusta esto pero debemos ya

resultados exigimos resultados menos planes menos proyectos menos papel y sobre todo más resultado menos sufrimiento para los niños

que cada vez que leemos algo de educación es para llevarnos casi casi un tortazo el último el de ayer

porque los hay los hay porque usted solamente presenta siempre

una de las actuaciones más relevante diseñada hasta el momento tiene que ver con la necesidad de realizar un seguimiento cercano del desarrollo infantil

cuya primera pase denominada vigilancia rutinaria del desarrollo se puso en marcha

y extendiéndose posteriormente a aulas de cuatro y cinco años por lo cual también tuvimos reconocimiento internacional el objetivo es detectar tempranamente posibles alteraciones de desarrollo que puedan generar necesidades específicas de apoyo educativo las altas capacidades incluidas

toda una batería de actuaciones que corroboran nuestra apuesta por la defensa y atención a la diversidad dirigida especialmente al alumnado de las altas capacidades objeto de su pregunta eskerrik asko uriarte

y de las libertades de los vascos tela eta

cada vez menos democrático todo absolutamente todo vale uno de los mayores peligros

es que se detiene el desarrollo cultural de todo un pueblo

a este paso no va a crecer ni una brizna de creatividad lastradas como están las personas que crean sean escritoras sean actores titiriteros o

y hablando de libros nacho carretero fariña un libro secuestrado por orden judicial por cierto un ejemplo

y ya que hablamos de marcos hablemos de cuadros santiago serra presos políticos en la españa contemporánea obra que usted no pudo contemplar el pasado viernes en arco su delito

cuya salida de prisión ayer se cumplieron dos años y que además de ser una condena injusta sufrió la censura política de poder ser elegido para estar en esta cámara y ya que hablamos de cámaras

ya que no podemos olvidar las actrices vascas como itziar ituño o miren gaztañaga

humanos lo mismo que le pasó unos años antes al actor gotzon sánchez sabe usted señor consejero saben ustedes

los últimos datos recogidos por casos relacionados con la libertad de reunión y de expresión ni uno ni diez ni ehun treinta y dos mil sanciones en dos mil dieciséis por casos

ciento catorce personas por enaltecimiento del terrorismo saben todos y todas ustedes cuántas condenas antes del cese de la actividad armada de eta antes de esa fecha solo hubo una condena por enaltecimiento del terrorismo en este sentido una única condena valtonyc pablo hasel

siguen sufriendo censura y prohibición de sus conciertos todos ellos al igual que los chikos del maíz esos que cantan por cierto terrorismo es manuel fraga asesinando trabajadores en vitoria

a todos ellos les décimos seguid componiendo actuando seguir incordiando seguid molestando

nos ha sorprendido y nos preocupa y mucho además que esta misma semana e i te be haya censurado

de que contiene algunas expresiones que denotan un contenido político evidente por lo tanto por un lado con esa afirmación la dirección de e i te be está admitiendo que estamos ante una censura política y eso

para nada avala dicha decisión es un error un grave error beltza

pero lo peor de todo es que se haya podido llegar a esta situación y me gustaría saber señor consejero qué opinión le merece a usted

de e i te be ya que este tipo de decisiones nos hacen daño como sociedad me gustaría conocer cuál es su opinión

de esta cuestión y la decisión que ha adoptado la dirección con la censura de esta cuña radiofónica nos hacen daño como sociedad señor consejero mina

kuña radiofoniko horretara porque la dirección lo que ha esgrimido es recomendar eliminar la siguiente frase y como usted bien ha dicho las cosas hay que llamarlas por su nombre y me gustaría saber en la frase el desarme de una organización militar con la ayuda de la sociedad civil uno

luego unos dirán que fue revolucionaria otros dirán que fue terrorista pero es mentira

dónde hay ahí un contenido político es mentira que el desarme se dio con la sociedad civil

con la ayuda de la sociedad civil es mentira eso señor zupiria tres

más inmovilistas cualquiera de ustedes pongan en google ahora mismo urkullu inmovilismo a ver a qué hace referencia señor urkullu

por lo tanto tomarnos el pelo por favor no y usted como consejero de cultura y como máximo responsable político de e i te be

porque cuando más se alargan este tipo de situaciones mayor daño nos hacen como sociedad la censura es la herramienta de los que tienen la necesidad de ocultar realidades ante sí mismos y ante los demás su miedo es solo su incapacidad para hacer frente a lo que es real y no puede expresar ninguna rabia contra ello eso se lo aseguro sino

mila esker señora presidenta buenos días a todas las parlamentarias

son una realidad en euskadi sobre todo en los campos de futbol llevamos mucho tiempo contemplando cómo se suceden los insultos peleas agresiones

en el contexto de la celebración de partidos de fútbol masculinos de alta competición en nuestra comunidad

el departamento de seguridad abrió ochenta y dos expedientes por infracciones previstas en la ley contra la violencia en el deporte de dos mil siete ochenta a espectadores y dos más

se concentraron en el fútbol cuyos partidos coparon el noventa y seis por ciento de las incidencias setenta y nueve casos por solo

cuarenta y seis aunque en álava hubo una proporción importante veinticuatro el doble que en gipuzkoa que fueron doce en febrero de ese mismo año en dos mil dieciséis todas recordamos la pelea que se produjo antes de un partido de la europa league entre grupos de hinchas club de bilbao y del olympique de marsella las imágenes de los

no son precisamente un ejemplo de los valores actitudes y comportamientos que desde el deporte debemos desarrollar e impulsar estamos preocupadas porque desde el dos mil dieciséis este tipo de exaltaciones de odio y violencia que se amparan

están incrementándose de manera exponencial solo en el último año de febrero de dos mil diecisiete hasta febrero de dos mil dieciocho han sido varias las ocasiones en las que se han producido importantes incidentes relacionados con partidos de fútbol profesional en euskadi

ultras del alavés y barcelona se enfrentaron en una batalla campal en vitoria y ese mismo mes

de incidentes entre aficionados del athletic y del apoel de nicosia

agredió a un vecino de bilbao en plena calle en octubre del mismo año se produce una batalla campal en vitoria

que ni siquiera se enfrentaban en el terreno de juego y que acabó con varios heridos

y podríamos seguir citando diferentes altercados y comportamientos violentos que han tenido lugar dentro del entorno de los espectáculos deportivos en algún punto de nuestra comunidad autónoma en los dos últimos años los equipos con aficiones ultras con actos violentos han dejado muy malos recuerdos

en la competición europea de los últimos años se recuerdan episodios de incidentes con aficiones ultras el más reciente ha tenido lugar hace una semana

una terrible consecuencia con el fallecimiento de inocencio alonso

natural de ermua que participaba en el operativo especial por los enésimos incidentes en bilbao y vinculados al fútbol especialmente a los partidos masculinos de competición europea unos incidentes violentos que comenzaron con anterioridad en vitoria y que contaron con un clima de confrontación alentado por las redes sociales y en diferentes plataformas de internet que proyectaban esos más que previsibles violentos los ultras rusos y vascos absolutamente descontrolados dieron rienda suelta a la violencia arrancaron adoquines y lanzaron bengalas y cohetes

la consejera de seguridad la señora beltrán de heredia reclamaba una reflexión profunda sobre la violencia en el deporte

episodios de violencia o de la propia federación de fútbol han indicado que hay que endurecer las medidas y abordar el problema de la violencia en el deporte desde la concienciación y la sensibilización de todas las personas

en este caso y por supuesto la implicación y coordinación de las instituciones y de las entidades deportivas es imprescindible y desde elkarrekin podemos entendemos que esa reflexión hay que realizarla también desde la dirección de actividad física y deporte

más allá de las necesarias intervenciones de la ertzaintza la prevención de este tipo de fenómenos es fundamental

de la práctica deportiva y la actividad física como fuente de salud integración cooperación y superación que facilite la cohesión social y sirva como herramienta para la lucha contra la desigualdad la violencia la exclusión o la rivalidad mal entendida para ello es imprescindible la adopción de estrategias de prevención

en torno al deporte y más dentro del deporte profesional ya que en la sociedad en la que vivimos lo que pasa antes durante y después de los partidos de fútbol

es referencia y ejemplo ante los ojos de la ciudadanía de quién es la responsabilidad

la presencia de radicales en los partidos de fútbol qué medidas deben tomarse estas son algunas de las preguntas que la sociedad vasca se plantea como testigo de repetidos episodios de violencia

y que nos incumben y afectan de una forma u otra a todas nosotras estamos preocupadas ante el aumento en euskadi de acontecimientos donde el deporte solo es una excusa y la violencia se convierte en la verdadera protagonista nos gustaría saber

actuaciones tiene previsto adoptar el gobierno vasco para prevenir la violencia ligada al deporte concretamente con el fútbol profesional asimismo nos gustaría saber qué papel juega en todo esto el comité vasco contra la violencia en el deporte kirolalde un órgano creado en dos mil cinco por el gobierno vasco

que comenzó su andadura con el nombramiento de sus primeros componentes y con su primera reunión el diecinueve de octubre de dos mil cinco

por personas y entidades del deporte vasco desde el gobierno vasco y las diputaciones incluyendo las federaciones clubes deportivos representantes del estamento arbitral representantes de la universidad deportistas

los objetivos fundamentales de este comité son proporcionar información sobre el estado de la violencia en el deporte vasco fomentar la buena práctica deportiva prevenir actitudes y comportamientos violentos y apoyar la educación en valores vinculados a la práctica deportiva

ya que aglutina a todos los agentes implicados en la lucha contra la erradicación de la violencia en el deporte

de prevención ante actitudes y comportamiento violentos que se produzcan en el ámbito del deporte en euskadi sin embargo

comprueba que en el año dos mil once la entonces consejera de cultura la señora

a la designación y composición del comité en cuanto a las personas que lo conforman pero no en cuanto a las instituciones que representaban

no encontramos ninguna referencia en siete años a las personas que componen este órgano

que tienen representación en él por otro lado es complicado acceder al acta de la última reunión realizada por este comité

cuándo ha sido la última vez que se ha producido una reunión del comité vasco contra la violencia en el deporte y cuáles han sido las cuestiones abordadas en ese encuentro

y el suministro de datos actualizados que nos permitan obtener una fotografía de la realidad en torno a la violencia en el deporte en nuestro territorio a pesar de esto

sobre hábitos deportivos y violencia en la práctica del deporte data del año dos mil diez ha sido este el último estudio que ha elaborado kirolalde nos gustaría saberlo

y se elaborase un informe ahora mismo con todos los acontecimientos y episodios de violencia que se han sucedido últimamente en este mismo estudio de dos mil diez puede verse que la gran mayoría de la sociedad vasca el sesenta y siete por ciento consideraba hace ocho años este tipo de comportamientos muy graves

estribaban fundamentalmente en la falta de educación el fanatismo isiltasuna es aquí en tareas de prevención donde tanto nos queda por hacer

los programas escolares y la formación a las diferentes profesionales son herramientas fundamentales en la erradicación de la violencia sin embargo la última campaña que consta en la página web

dos mil doce ha puesto kirolalde en marcha alguna campaña de concienciación y sensibilización desde el año dos mil doce

y las acciones y programas que se han llevado a cabo así como los resultados y el impacto que han tenido por todo esto nos gustaría saber si usted

ante un problema grave en lo que se refiere a la violencia en el deporte y qué medidas estrategias campañas y acciones

para conseguir que la violencia no sea la noticia en el contexto de la celebración de los eventos deportivos en euskadi y más concretamente en el fútbol masculino de alta competición y lo que nos parece más importante qué medidas estrategias campañas y acciones tienen previsto impulsar

en lo referente a la prevención de la violencia en las actividades deportivas de nuestro territorio eskerrik asko eskerrik asko garcía

graves disturbios que grupos de violentos provocaron el pasado veintidós de febrero en bilbao y quiero sumar también

a la de todas esas voces que se han manifestado contra los violentos incidentes que lamentablemente vivos en las cercanías de san mamés

y creemos en el departamento que esos comportamientos violentos

de lo que es la actividad deportiva y creemos más bien que se enmarcan en el ámbito relacionado con la seguridad como pudimos comprobar para algunos el partido entre el athletic y el spartak

un enfrentamiento de carácter fascista entre supuestos aficionados y cometer actos violentos

concretamente a su interpelación en primer lugar debo informarle de que el gobierno vasco está trabajando en un programa socio educativo de prevención de la radicalización violenta en todas sus manifestaciones que incluye también la radicalización violenta vinculada a comportamientos fanáticos en torno al mundo del futbol este programa es una consecuencia del trabajo de prevención ante diferentes expresiones violentas que estamos desarrollando como gobierno dentro de una reflexión más global y más general para prevenir

estará preparado en unos meses y está siendo liderado desde la secretaria general de derechos humanos convivencia

el programa parte de la tesis de que la radicalización violenta en sus diferentes expresiones tiene en sus orígenes casuísticas de origen universal

en sus consecuencias efectos en la conciencia personal e individual especialmente en edades tempranas su tratamiento por lo tanto también debe ser de carácter transversal y requerirá la colaboración de distintos agentes sociales y educativos también

de los de los clubs de futbol en segundo lugar esta misma semana se han reunido las direcciones de actividad física y deporte de nuestro departamento y la de juego y espectáculos del departamento de seguridad para analizar desde el ámbito del deporte

lo ocurrido en torno a los acontecimientos de la semana pasada la consejera de seguridad dará más adelante algunos detalles de las medidas que se han tomado al hilo de esta cuestión

hace ya algunos años un protocolo de colaboración en materia de lucha contra la violencia el racismo la xenofobia y la intolerancia en el deporte y este

se hizo desde la perspectiva de que el deporte debe tener una función de promoción de valores como el respeto la tolerancia la deportividad la no discriminación de las personas es decir valores que chocan frontalmente

la semana pasada en virtud de estos principios y valores que se quieren fomentar y conscientes de la relevancia que en nuestra sociedad el deporte tiene

asumimos la necesidad de coordinar todos los esfuerzos medios materiales y personales para garantizar la seguridad de los partidos dentro de las instalaciones donde se desarrollan este protocolo es de aplicación en todas las competiciones que se celebran en la comunidad autónoma de euskadi

de la ley diecinueve barra dos mil siete del once de julio contra la violencia el racismo la xenofobia y la intolerancia en el deporte se aplica a todos aquellos encuentros deportivos en los que participan equipos

primera división segunda división a segunda división b así como en todos aquellos encuentros deportivos organizados o autorizados por cualquier federación de ámbito estatal autonómico o territorial que a juicio del departamento de seguridad así lo exijan por razones de prevención de la seguridad ciudadana

asume tareas de planificación dirección organización coordinación general y control de los servicios de seguridad con ocasión de los espectáculos públicos mencionados

para cada uno de los eventos el criterio de esta personas prevalecerá en la resolución de incidentes violentos que puedan suceder

de los responsables y el personal dependiente de la organización de cada competición además junto a este protocolo que le he comentado se ha desarrollado un decálogo de buenas prácticas

y le voy a leer los diez mandamientos de este decálogo

el respeto es la base del deporte respeta al equipo visitante a las personas aficionadas y seguidoras del mismo como lo haces con las que siguen a tu equipo segundo

recuerda que la tolerancia detiene la violencia cuarto estás en un recinto deportivo con más gente

puede influir en las demás personas quinto tú eres la imagen de tu equipo recuérdalo sexto

séptimo el personal de seguridad está para proteger a todas las personas también a ti

y respétalo octavo acata las reglas del juego dentro y fuera del terreno de juego noveno si quieres ver juego limpio en el campo

y décimo apoya a tu equipo y disfruta del espectáculo estos son los valores que pretende fomentar

además debo señalar que se han promovido campañas publicitarias con los mensajes en contra de comportamientos violentos racistas xenófobos e intolerantes o no reglamentarios en el deporte se han colocado carteles y dípticos con el decálogo de buenas conductas en el deporte para su colocación y distribución

y a cuantos lugares se estime pertinente por añadir alguna acción más en la última final de copa en la que intervino un equipo vasco el alavés

y en contra de la violencia con el fin de sensibilizar a ambas aficiones por otra parte hace quince días aproximadamente se ha organizado

la primera llevó por título actitudes y comportamientos violentos en torno a la práctica del deporte y los espectáculos deportivos

ante la violencia en torno a la práctica y a los espectáculos deportivos por lo tanto se trata de una cuestión en la que no hay dejadez otra cosa es que se acierte o no en los enfoques determinados y si hay capacidad o no para llegar

de todas formas se continuará trabajando de forma intensa y en la prevención y creo que con la experiencia de estos años podemos afirmar que el trabajo da sus frutos

y hablo de desplazamientos de decenas de miles de personas el comportamiento de la afición vasca siempre ha sido ejemplar las aficiones vascas han sido incluso felicitadas por parte de las partes anfitrionas no obstante y lo hemos podido comprobar la semana pasada no es sencillo evitar que

a la que a menudo el deporte ni siquiera le interesa y creemos que se mueve por razones de otro cariz opte por tratar de convertirse en protagonista en situaciones excepcionales con todo seguiremos trabajando en la prevención para que los comportamientos en torno a las citas deportivas estén ligados a los valores del deporte porque una abrumadora mayoría de la sociedad vasca

el tipo de comportamientos que hemos citado cada vez son menos quienes tratan de justificar o relativizar este tipo de comportamiento

desgraciadamente aún existen algunos por lo tanto seguiremos trabajando en la línea de su prevención eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna

le parece a usted que se está realizando una gestión responsable y adecuada

quizá en mi primera intervención no he sido lo suficientemente clara spartak de moscú

racingo de santander gasteiz octubre del dos mil diecisiete apoel de nicosia bilbao febrero del dos mil diecisiete

abril del dos mil dieciséis olympique de marsella bilbao febrero del dos mil dieciséis real betis gasteiz abril del dos mil cinco

real madrid donostia agosto del dos mil trece amistoso de euskadi bolivia diciembre del dos mil doce schalke cuatro bilbao abril del dos mil doce un muerto y ustedes

después de siete años siete años y un muerto yo creo que el trabajo que tenía que hacer el departamento no se puede resumir en tenemos un programa en leer los diez puntos del decálogo que ustedes

en carteles y dípticos y han tenido que esperar a que muera

esos incidentes se han producido cuatro de ellos cuando usted era el máximo responsable

que la violencia y los incidentes en los espectáculos deportivos son una realidad en euskadi sobre todo en los campos de futbol desgraciadamente los lamentables acontecimientos de los últimos días así lo avalan

grave en lo que se refiere a la violencia en el deporte y usted ha respondido de manera afirmativa

que vuelvo a especificar no se reúne desde hace siete años cito literalmente pone lo siguiente aunque no nos encontremos con un problema que pueda considerarse grave

en qué quedamos señor zupiria existe o no existe un problema con la violencia en el deporte vasco

y es hora de abordarlo no con un programa que ya haremos sino con lo que teníamos que haber hecho qué análisis se ha realizado de la situación y del papel que juegan los diferentes agentes que participan en el ámbito deportivo quién coordina y controla lo que hacen los clubs deportivos las federaciones el colectivo arbitral o las diferentes peñas asociaciones que representan a las aficionadas

desde el gobierno vasco esta semana se ha hablado de unas medidas de control ya existentes según la propia señora heredia se firmaron a lo largo del dos mil dieciséis una serie de convenios con los clubs vascos de élite

para colaborar en la prevención de la violencia en el deporte el acuerdo se ha hecho extensivo también a varias federaciones autonómicas

y por qué si existe un comité vasco contra la violencia en el deporte

y las federaciones que firman de forma paralela y duplicando espacios en estos convenios cuál es la situación de otros agentes del sector

porque si tenemos un órgano que no utilizamos si tenemos un órgano que no se reúne entiendo yo que no son fluidas y tenemos que crear una serie de convenios cuando los acontecimiento nos superan no es kirolalde una herramienta eficaz para la coordinación y desarrollo de políticas de prevención contra los comportamientos y actitudes violentas

me gustaría saber qué actividad ha realizado el comité vasco contra la violencia en el deporte que haya facilitado

de la violencia en el deporte hay estudios de dos mil diez hay campañas de dos mil doce la última memoria anual es de dos mil doce no entendemos cómo ahora me habla usted de un programa que van a desarrollar detállenos por favor aparte de aquella campaña de dos mil diez qué campañas se han realizado en materia de fomento desarrollo y formación de valores en el deporte federativo o en centro escolares donde tanta incidencia tiene

para finalizar señor zupiria solo quiero decirle que tienen ustedes una oportunidad de impulsar medidas y acciones concretas que sean útiles y eficaces en lo que respecta a la prevención y la erradicación de la violencia en el deporte

de todos los agentes para que consigamos que acudir a un partido de futbol

donde el deporte la superación la integración la cooperación y el juego en sí mismo sean los verdaderos protagonistas y la violencia y sus diferentes manifestaciones queden excluidas completamente lo que no podemos es empezar ahora a realizar el trabajo que no se ha hecho en los últimos siete años
porque luego nos encontramos en la situación que nos encontramos pónganse a trabajar eskerrik asko eskerrik asko

señora garcía yo creo que los acontecimientos que se vivieron la semana pasada en bilbao no tienen nada que ver con lo que sucede todos los fines de semana durante nueve meses al año en los cientos de estadios de futbol que existen en nuestra comunidad autónoma miles

que los valores que se transmiten en esos partidos no tienen nada que ver con lo que vimos la semana pasado creo que no estamos acostumbrados a ver

o sea creo que eso no refleja la realidad del deporte en nuestra comunidad autónoma y eso lo sabe usted como yo ahora si queremos aprovechar este viaje para mezclarlo todo pues muy bien lo podemos hacer pero eso no es así

años que en esta comunidad a través del gobierno vasco

de los ayuntamientos de las federaciones en todos los niveles se impulsan programas educativos en el ámbito del deporte también los que existen señora garcía porque vuelvo a insistir creo que esos acontecimientos no reflejan lo que es la vida deportiva de este país y no se empeñe usted en querernos demostrar lo contrario porque es que no es así no es así

así creo que esa no es la realidad que tendremos que

pero con lo que respecta a nosotros en este país para saber qué elementos se están moviendo en torno

que van más allá de la seguridad que tiene que ver con la formación que tiene que ver con la educación y creo que se ha hecho y se va a tener que seguir haciendo

de separar los conceptos y los acontecimientos porque

porque desgraciadamente en nuestra sociedad acostumbrada a muchas expresiones de violencia hay

y formas de actuar que no encajan con lo que debe ser la convivencia y el comportamiento de una sociedad democrática y civilizada pero sucede y no será porque no se han hecho cosas

habrá que seguir identificando bien cuáles son las políticas que hay que promover

desde los clubs de futbol desde la escuela desde las federaciones desde los clubs de primera y de segunda desde las instituciones

y sin que nosotros hagamos ninguna dejación de nuestra responsabilidad muchas gracias eskerrik asko zupiria jauna gai zerrendako

buenos días gracias presidenta consejeras consejeros señores parlamentarios bien efectivamente vamos a enfocar

tratar de darle un enfoque efectivamente a través de darle contenido a este comité vasco contra la violencia en el deporte qué puede hacer

está previsto que haga o que haya hecho porque estamos hablando de una cuestión que es cultura de la convivencia aparte integrada en el deporte

y no es un asunto fácil ya se está demostrando que no es un asunto fácil el señor consejero ha tratado de decir efectivamente desde la normalidad y está claro

equipos y a los deportistas son ejemplares

que hace que se escondan personas detrás de una camiseta con ideas políticas radicales ultras de no convivencia y eso es un problema

que abordarlo y sí lo hemos identificado lamentablemente lo hemos identificado de nuevo la semana pasada

habla de la violencia habla de que se impulsarán instrumentos de lucha ante la violencia en competiciones deportivas es una ley que habla la ley del deporte habla de represión

las palabras contundentes la ley vasca del deporte en relación con lo que hay que hacer con los violentos alrededor del deporte en torno al deporte qué hay que hacer

enfocar esa cuestión la tenemos que enfocar como elemento vuelvo a decir de valores y de convivencia

donde se puso la expresión el otro día seguramente serían en muchos jóvenes en muchos niños y niñas y gente que sigue el deporte y que sigue al athletic y vieron un ejemplo de lo que no puede ser pues eso es lo que hay que atacar por eso mismo yo creo que utilizando

se puede avanzar espero que nos explique un poco porque habla de las cuestiones que puede

expedientes incluso a espectadores que puede incoar así que en ese sentido entendemos que

señor barrio voy a hablar de lo que habla la ley y voy a hablar de lo que hacemos

nueve barra dos mil cuatro son fundamentalmente de carácter preventivo y de sensibilización

una realizar y aprobar informes y estudios sobre las causas y efectos de la violencia en el deporte y promover acciones concretas dos elaborar recomendaciones a clubs agrupaciones federaciones deportivas y demás entidades o personas organizadoras de competiciones deportivas

y cuatro impulsar la colaboración con las instituciones u órganos de naturaleza pública o privada que persigan fines análogos especialmente con el consejo vasco de espectáculos públicos y actividades

en ejecución de dichas funciones las actuaciones del comité hasta ahora se han centrado principalmente en el trabajo preventivo ya que la competencia sancionadora

los incidentes ocurridos en bilbao el pasado jueves veintidós de febrero se enmarcan en las infracciones previstas por la ley de julio del año dos mil siete contra la violencia el racismo la xenofobia y la intolerancia en el deporte

las direcciones de actividad física y deporte y de juego y espectáculos

es a esta última a quien corresponde la sanción de las infracciones derivadas de actuaciones violentas y voy a hablar de expedientes sancionadores iniciados incoados relativos a eventos de fútbol los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete hubo un total de ciento noventa y tres expedientes sancionadores

fueron insultos y amenazas en veintitrés ocasiones agresiones

participación en peleas y desórdenes públicos cuarenta y dos expedientes en cuanto a la cuantía total de las sanciones que se impusieron estas se encuentran entre los ciento cincuenta y los tres mil quinientos euros

uno y doce meses en varios casos en esta misma línea las direcciones de actividad física

y de juego y espectáculos del departamento de seguridad hemos acordado realizar nuevas campañas de comunicación que se añaden a las que se han realizado hasta ahora asimismo

dirigida al entorno del fútbol al comienzo de la próxima temporada de liga

de todos los estamentos implicados se tomen cartas para evitar la explosión de actos violentos en acontecimientos y actos deportivos o en torno a ellos

sí gracias consejero efectivamente el comité tiene trabajo tiene mucho trabajo que hacer y efectivamente en la búsqueda de limitar desde luego a cero esas expresiones de intolerancia nosotros queremos traer la reflexión al parlamento vasco también hemos presentado una iniciativa que quiere que en

que ha sido la expresión última y cómo neutralizarla y que esos acontecimientos

hemos avanzado mucho en lo que es el espectáculo deportivo se prohíbe beber se prohíbe fumar lo hemos hecho

pues aquí tenemos una asignatura donde usted señor consejero fundamentalmente porque es un tema de seguridad en parte pero fundamentalmente es un tema de cultura de cultura deportiva tenemos que avanzar desde luego las porras extensibles de los ultranacionalistas con la camiseta del athletic y los puños americanos eso tiene que desaparecer esa cultura todavía violenta que tienen algunos grupos ligados a la izquierda abertzale tiene que desaparecer ligada además al deporte escondido detrás de la camiseta del athletic

algo falla algo falla aquí algo falla y usted como consejero de cultura tiene que neutralizar porque la expresión es la radicalidad
de esta parte muchas gracias eskerrik asko barrio jauna zupiria jaunak

gracias señora presidenta buenas tardes ya a todos como se ha venido diciendo aquí el pasado jueves

el partido entre el athletic y el spartak de moscú un partido en el que lo hubiera debido de quedar es el resultado deportivo pero en el que este fue lo de menos un ertzaina inocencio alonso muerto y desde aquí la solidaridad mía propia y de mi grupo con su familia como digo un ertzaina muerto nueve ertzainas heridos cuatro de ellos con baja laboral más heridos fuera de la ertzaintza

miles de aficionados y vecinos impactados por los enfrentamientos y millónes de ciudadanos una vez más viendo la imagen de bilbao vinculada a la violencia y vaya desde aquí

el resultado del partido absolutamente trágico

como digo de un agente de la ertzaintza de un miembro de la brigada móvil

en medio de una batalla campal entre los salvajes porque no se les puede llamar aficionados entre los salvajes radicales de ambos equipos de ambos pero sobre todo de los radicales de herri norte porque señora consejera usted decía a la mañana siguiente

a estas alturas nos viene a decir que debemos fijarnos en los radicales

no sabemos lo que tenemos en casa usted que se estrenó en el cargo en un partido

en los que pudo ocurrir una desgracia en la que los agentes fueron acorralados

porque además se les impidió por imagen llevar casco y escudos antidisturbios

me quiere decir a estas alturas que no tiene investigados que no tiene datos de los hinchas radicales de aquí

cómo puedes permitir que equipos con estas aficiones jueguen en tus competiciones y qué hacemos con los aficionados de herri norte

donde nunca pasa nada donde los hinchas radicales y violentos los son menos porque son nuestros radicales y violentos porque los hinchas violentos del athletic

le han dicho algunas aquí lo han protagonizado con seguidores del olympique de marsella

fuentes policiales aseguraron que fueron los seguidores radicales del athletic los que comenzaron a lanzar bengalas y cohetes a los aficionados rusos que habían llegado

del estadio de san mamés escoltados por la ertzaintza todos sabemos desde hace tiempo

de la existencia de esta hinchada radical la tiene o no la tiene señora consejera supongo que sí pero sobre esa hinchada no se actúa

cuál es la razón política o de otra índole por la que no se actúa el jueves pasado

de una hinchada radical en el que se vio meter una serie de elementos para atacar y sin embargo

por qué en cambio eso sí dos horas antes del partido

de la manifestación antifascista convocada y se requisaron porras extensibles barras metálicas

todo muy propio para ir a ver el fútbol qué se les ha hecho cuántos procedimientos abiertos hay a cuántos se han identificado en los videos se ha sancionado a alguien a cuántos debemos

porque el pasado jueves hubo un colegio sin clases los hosteleros no pudieron sacar las terrazas hubo mobiliario urbano destruido esto se puede admitir por un partido de futbol

y mención aparte señora consejera el motivo también de esta interpelación es la organización del operativo

es decir un operativo bien organizado con un número de agentes suficientes

y sé lo que me va a contestar señora consejera porque lo dijo en un medio de comunicación que estuvo muy bien organizado que fue un operativo eficaz

salvo usted y su equipo nadie más lo ve hubo batallas campales por no citar un fallecido fue un operativo que volvió a ser insuficiente y que volvía a estar mal organizado

quinientos agentes sin embargo eso se negó desde los sindicatos de la ertzaintza que señalaron que había doscientos dieciséis agentes

y ciento cincuenta de protección ciudadana en la explanada de san mamés en el momento de la confrontación de ambas aficiones radicales es cierto que solamente había quince agentes

el hecho de que el número de agentes fuera insuficiente provocó una sobre carga de estrés

a la que se vive ya de normal un operativo

cuando estos como le he dicho antes han sido los causantes de gran parte de los disturbios que se vienen produciendo en bilbao en todos los partidos

entre ambas aficiones había padres con hijos que simplemente iban a ver el futbol el lanzamiento de bengalas de adoquines y de otros objetos les puso en grave riesgo usted cree que con quince agentes si era los que había se puede hacer frente a ellos

que mantiene un espacio de no contacto y en el que se utilizan instrumentos como por ejemplo los lanzadores de pelotas de

muchos más agentes más agentes que los posibles manifestantes ustedes parecen haber elegido un híbrido

cuando en muchas ocasiones se han demostrado insuficientes incluso se preguntan por qué se les obliga a llevarlos a portarlos cuando no se autoriza en ningún caso a utilizarlos ello pudiera ser debido a que han elegido ustedes el segundo modelo

pero el número de agentes entonces es claramente insuficiente días previos se decía que iban a venir dos mil aficionados rusos gran parte de ellos violentos

a trabajar a doscientos quince agentes de la brigada móvil y ciento cincuenta de seguridad ciudadana en un cuerpo a cuerpo

de alto riesgo y el operativo no era suficiente sin contar con que un día de partido cuyo riesgo era tal que incluso no podía haber clases en un colegio cercano el viceconsejero y el director de la ertzaintza se fueron a madrid a una feria

e hinchas heridos con un ertzaina muerto con graves disturbios a las nueve de la noche se cierra la mesa de crisis

estuvo muy bien organizado le falta añadir que es que somos los más altos los más fuertes los más guapos que por autocomplacencia que no quede y si esto es así yo le pregunto señora consejera

si este estuvo perfectamente organizado el del día quince de marzo que juega el athletic contra el olympique de marsella que hace dos años sembraron el caos en bilbao

que metieron bengalas en el campo lo van a organizar exactamente igual esperamos que la situación de estrés de sobrecarga laboral y emocional no vuelva hacer que un agente pierda la vida como le ocurrió a inocencio alonso pero cuántos heridos va a haber

hubo nueve agentes heridos está dispuesta asumir

el operativo de la misma manera aunque haya heridos

porque sabe lo que pasa señora consejera que entre los agentes hay una sensación y es que al departamento de seguridad que haya agentes heridos no les importa si los heridos son los agentes de la ertzaintza entonces el operativo a pesar de esos heridos

responsable de los disturbios los radicales pero desde luego responsable del operativo usted ayer protestaban los agentes aquí no por subida de sueldo como le gusta decir a usted no protestaban porque ya no pueden más porque esta ha sido la gota que ha colmado el vaso y desde luego luego me referiré a ello no es de recibo que ustedes que el señor

eta zigorgarria da lo que ayer protagonizaron a este parlamento vasco cerca de doscientos cincuenta ertzainas fue

denunciable y sancionable intolerable porque viene además de donde viene de los que se tildan de representar a los

y no quiero pecar de injusta estaba el sindicato mayoritario y también los dos sindicatos minoritarios pero no estaba buena parte de la representación sindical de la ertzaintza

a cada cual lo que le corresponde pero es evidente que los que

obstaculizando gravemente el acceso de muchos y muchas de ustedes y el paso de ciudadanos y ciudadanas

a las instituciones que velan y garantizan sus derechos y lo de ayer además es denunciable denunciable porque incumplieron las normas más básicas

en este tipo de concentraciones y manifestaciones públicas

no son una excepción frente a la ley por tanto

tendrá sus consecuencias a quienes convocaron la concentración se les aplicará la ley de seguridad ciudadana con las sanciones administrativas que correspondan

sobrepasaron el cordón de seguridad que se aplican en estas concentraciones

y espero que tomen nota de ello

y denuncias que su partido ha puesto a disposición solamente de la ertzaintza

isiltasuna que no era este el tema con el que quería comenzar

jarraitu sailburu andrea eskerrik asko presidente andrea pero también quiero decirle que no era

en bilbao en el acto de entrega de los diplomas y las medallas al merito en protección civil y en la atención a los casos de emergencia

representaban en aquel acto valores de valentía entrega trabajo en equipo y solidaridad y sobre todo quise expresar en público lo que la víspera puede hacer en privado con la familia que no era otra cosa que manifestar una vez más el dolor y la consternación del gobierno del departamento

por el fallecimiento de inocencio alonso agente de la brigada móvil en acto de servicio

en los prolegómenos del encuentro entre el athletic y el spartak de moscu en un partido de futbol

expresé y expreso aquí también el reconocimiento y la admiración personal e institucional por lo que él

a la ciudadanía para la ciudadanía vasca pero evidentemente no es

con esa intolerable e inaceptable actitud ante los y las parlamentarias ante el gobierno y ante el lehendakari ertzaintzako lan baldintzak

astearterako deitu zegoela ertzaintzako kontseilua ere así es los sindicatos firmantes del

saben desde la semana pasada que el departamento de seguridad tiene convocada la mesa paritaria para tratar los temas laborales de mejora de las condiciones salariales y de horario

por dos convocatorias ya la asistencia a esta paritaria

también saben los sindicatos que el próximo martes teníamos convocada

para el próximo martes consejo de la ertzaintza en el que presentaremos el expediente para la declaración de acto de servicio y concesión de medalla al reconocimiento a la labor policial

en acto de servicio cuando formaba parte de un dispositivo de gran envergadura

en el entorno del encuentro de fútbol de esa noche dispositivo en el que iba a intervenir junto a otros compañeros para controlar los incidentes que seguidores de ambos equipos empezaban a generar lo que todos y todas hemos podido ver en imágenes incidentes que no duraron mucho

neutralizó con rapidez y eficacia pero que no dejan de ser preocupantes intolerables condenables siempre para el consejo de la ertzaintza también están planteados

para la mejora en todo aquello en lo que haya que mejorar es importante que cada sindicato deje clara también su posición sobre la manera de modernizar la brigada móvil pero también sobre lo que ocurrió ayer frente a este parlamento

tenemos la obligación de saber qué normas legales y de convivencia y qué reglas de juego democráticas

necesitamos saber como departamento y como gobierno y como sociedad qué garantías de seguridad están dispuestos a darnos quienes hablan

que nos expliquen también algunos sindicatos con pelos y señales

porque no quieren participar en los operativos de seguridad del partido del athletic y del olympique de marsella necesitamos saber eso y lo sabremos

del partido del pasado jueves estuvo bien organizado estuvo bien planificado gracias a los trabajos

gracias a los trabajos de inteligencia y señora llanos no confunda un titular

toda la semana he puesto el punto sobre la necesidad y sobre el riesgo de ambas aficiones y me parece y me parece que usted debería corregir cuando habla de dos mil rusos que venían

fueran las personas todas ellas violentas y fueran a quemar bilbao

y por eso fue posible por eso fue posible requisar precisamente

señora consejera su respuesta ha sido inaudita

en primer lugar porque no me ha respondido en una cosa que ya le diré

como pocas veces hemos visto en esta cámara de verdad ha puesto usted en el mismo plan

de un ertzaina con las manifestaciones que se produjeron ayer aquí usted prácticamente ha amenazado a aquellos

porque lo que ayer hubo aquí fue una manifestación
isiltasuna una manifestación usted me dice que va a aplicar la ley de seguridad ciudadana contra

y no la aplica en otras ocasiones contra los radicales hasta este punto llega a querer contentar a los radicales de este país de verdad señora consejera y usted que haya dos sindicatos que ayer no estuviera allí no quiere decir que no hayan pedido su dimisión

lo mismo y se atreve usted a decirme que se sintió acosada pero si usted ayer estaba más arropada que los ertzainas que estaban en la explanada de san mamés

que había más gente que los que sí estaban acosados

en ese operativo tan bien organizado según usted de verdad usted

los que hemos vivido una situación de acoso y en bastante más soledad que en la que usted estaba ayer

y le voy a decir una carta que le han escrito

no se puede estar más seguro y criticaremos su trabajo pero nos jugaríamos el físico como lo hacemos cualquier otro día por cualquier ciudadano porque seguiremos siendo responsables seguiremos siendo policías esto le han escrito

y que según usted ayer tenían una actitud amenazante

dice usted que la operativa funcionó bien usted ya le digo debe de ser la única que lo piensa

que el operativo funcionó bien de verdad váyase a casa

que el operativo funcionó bien dedíquese a otra cosa pero no a organizar operativos porque ya le digo usted y su equipo

los únicos que piensan que el operativo estuvo bien

que usted viene manifestando desde el primer partido de anoeta en el año dos mil doce en el que pudo haber una desgracia es palmaria

mejorar es imposible rectificar es imposible organizar un operativo bien cuando ante una nefasta organización

usted lo único que contesta es que estuvo bien organizada se lo he dicho antes nueve

no le importan nada es un éxito con nueve agentes heridos

eso es un éxito así va a organizar el del olympique de marsella cuántos heridos va a haber cuántos heridos cuántos está dispuesta a asumir heridos de la ertzantza

muchos avisos antes pero a ver si ya en este

de verdad mire tiene usted una policía absolutamente profesional tiene usted una policía

de la que tiene que sentirse orgullosa pero que está organizada y dirigida de manera absolutamente nefasta
hágaselo mirar como le digo si el operativo es un éxito dedíquese a otra cosa eskerrik asko

eskerrik asko efectivamente parece que le ha llegado a usted una carta dirigida a mí antes que a mí misma la leeré el lunes

entre tanto como usted ya conoce señora llanos que de estas cosas hemos hablado

que sea necesario y que mejor se ajuste a las circunstancias del nuevo partido de liga europea el día quince en san mamés

ni usted ni yo sino las personas que saben los profesionales

personas con capacidad con experiencia con formación la ertzaintza cuenta con la jefatura

y evalúa este tipo de eventos por tanto insisto en lo que me ha oído decir muchas veces aquí

quienes tienen preparación quienes tienen experiencia quienes tienen capacidad y conocimiento para ello lo mismo el del día

como el próximo que organizarán para el día quince y en ello están en ello están trabajando trabajando de una forma coordinada y complementaria con los responsables del athletic

con la policía francesa con el ayuntamiento de bilbao con la policía local con la dirección de atención de emergencias y meteorología la dirección de juego y espectáculos

es decir es mucho el esfuerzo que se hace y los recursos que se destinan para ello pero exigimos que

se corresponsabilice también el athletic en este caso concreto

ley de espectáculos públicos y actividades recreativas pues lógicamente se reclamará la parte correspondiente a abonar por el dispositivo especial que hubo

es corresponsabilidad como fija la ley la misma que hemos pedido siempre desde la dirección de juego y espectáculos

de las categorías más importantes con relación a campañas de concienciación

y antidemocráticas en los espacios deportivos lo hicimos explícitamente en colaboración con el alavés y la liga de fútbol española como ya ha adelantado antes

en madrid entre el alavés y el barcelona y lo vamos a poner ahora en marcha en el athletic y no porque pensemos que son la pócima mágica sino que contribuye también para quienes quieren escuchar a garantizar la seguridad inportantea da elkarrekin lan egitea kirolaren inguruko indarkeriari

por eso nos hemos dirigido por iniciativa de la dirección de juego y espectáculos de este departamento de seguridad y la dirección de deportes del departamento de cultura a la uefa para mostrarles nuestra total disposición a colaborar

colaborar en todo aquello que pueda contribuir a promover y facilitar mecanismos y medidas oportunas para tratar de impedir entre todos

o practiquen la violencia se desplacen también para tratar de evitar que puedan

e impedir por tanto que tengan acceso a las entradas para dichos encuentros

por tanto señora llanos no centre tanto su atención en las reivindicaciones sindicales confíe

estoy orgullosísima de los profesionales que hay ahí tanto de quienes tienen que ejecutar los operativos como quienes diseñan los dispositivos por tanto no sé si a usted

al parlamento que los que atendieron de una forma profesional y solidaria los cientos de incidencias que ayer mismo hubo también en euskadi

en bilbao volveremos a contar con un dispositivo policial adecuado y ajustado a las necesidades ocúpese más como anunció ayer en su rueda de prensa o su partido en rueda de prensa de hacer frente

poner en marcha medidas eficaces para erradicar la violencia en el ámbito del deporte estoy convencida que todos juntos y juntas lo podremos conseguir eskerrik asko

buruz becerra jauna zurea da hitza egun on guztioi señora consejera en septiembre de dos mil diecisiete se
publicó el pliego de condiciones del contrato de adjudicación del servicio

y seis meses después sigue sin adjudicarse puede decirnos cuál es la razón eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea señor becerra se interesa usted por las razones por las que no se ha resuelto la contratación del servicio de atención de llamadas a emergencias al número de teléfono ehun eta hamabi sos deiak y la cuestión es muy sencilla

administrativas cuestiones técnicas administrativas se trata de un contrato importante no exento de complejidades técnicas acorde a las características y con la relevancia de los servicios de atención que abarca

exigente es exhaustiva es garantista del interés público y del respeto a los derechos e intereses de los licitadores sujeta por tanto a las normas de transparencia que exige la

y en este punto quería recordarle que la complejidad del expediente y de la contratación también radica en parte en el hecho de que abarca dos servicios por un lado

y por otro lado la atención a la ciudadanía sobre las incidencias de tráfico

estas dos cuestiones como usted puede imaginar y efectivamente como usted ha indicado se inicia el expediente de contratación el catorce de septiembre de dos mil diecisiete

más tarde de lo que hubiéramos querido la razón como ya le expliqué en la pregunta que me formuló el pasado diciembre de dos mil diecisiete

ajustándolo al nuevo convenio colectivo del contact center que se había publicado en el boletín oficial del estado

y que venía a mejorar las condiciones de los y las trabajadoras

en el perfil del contratante en cualquier caso decir que todo el procedimiento sigue avanzando que está ya en su fase final lo que nos puede llevar a formalizar el contrato en la segunda quincena de abril si no hubiera ningún tipo de recurso

el contrato no lleva seis meses vencido lleva más de dos años vencido

y más allá de cuestiones puramente administrativas parece que ustedes olvidan a veces que detrás de los contratos hay personas personas para las que

absoluta en el pliego de dos mil once se les olvidó incluir la subrogación y por lo tanto estas personas no tienen antigüedad desde dos mil doce no solamente no tienen antigüedad sino que no tienen futuro porque mientras no se adjudique porque mientras no se adjudique ese contrato esas personas no saben si van a seguir trabajando o no

que me gustaría que pudieran entender todos y todas en esta cámara

de precariedad porque mientras no haya un nuevo contrato

seguirán con las condiciones laborales lamentables que tienen hasta ahora apenas doscientos euros por encima del salario mínimo interprofesional

una de las últimas condiciones que pedían en su momento cuando pidieron empezar a negociar

día y medio seguido para estar con sus familias día y medio seguido para estar con sus familias no pueden ni siquiera negociar eso pero sabe lo que ha hecho la empresa mientras tanto les ha quitado la planificación anual ahora solo les da un plan de trabajo mes a mes con lo cual

usted no sabe si estará contratado pero ellas ni siquiera pueden saber si van a estar de vacaciones o van a tener días libres y esas son sus condiciones ahora y yo ya lo dije la primera vez el problema de esta cuestión uno de los problemas desde mi punto de vista es que el noventa por ciento de esta plantilla son

y una situación de interinidad y el próximo jueves ocho de marzo seguramente su gobierno el gobierno al que pertenece celebrará el día por todo lo alto y hablará de brecha salarial y estas trabajadoras de atención telefónica cobran el sesenta por ciento menos

eso es brecha salarial también no entre hombres y mujeres sino entre mujeres y mujeres

unas condiciones laborales indignas y miserables y no solamente no pueden

ni el ocho de marzo ni el resto de los días del año porque ustedes su gobierno

del cien por ciento y no tienen ni siquiera derecho de huelga y sabe qué es lo peor lo peor no es que ustedes desoigan al parlamento que por tres veces les ha afeado su conducta lo peor no es que ustedes digan como ha dicho usted de la ertzaintza que están contentas del trabajo de esa plantilla y sin embargo

lo peor es que se comporten así con personas que salvan vidas

me la pueden salvar a mí o se la pueden salvar a usted y mire desde el punto de vista político

e inadmisible la actitud del gobierno políticamente pero desde el punto de vista de un ciudadano incluso desde el punto de vista humano yo lo que le digo es que esta situación después de año y pico o de dos años a mí personalmente me produce una tremenda vergüenza

es en qué estado de tramitación está este expediente y nos tenemos que situar veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete en esa fecha una vez analizadas las tres propuestas que se presentaron las direcciones promotoras de la contratación tanto la dirección

tráfico emitieron el correspondiente informe de las propuestas y en base a ese informe

de las ofertas económicas presentadas clasificando de esta manera las propuestas y determinando

la empresa propuesta como adjudicataria en función de esa valoración fuera

ahora una vez superados todos los controles de la oficina de control económico el expediente con toda su documentación está nuevamente en manos de la mesa central de contratación mesa que ha solicitado ya a la empresa adjudicataria los certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias y en la seguridad social y el depósito de la fianza trámites que

y por tanto en una fase de contratación pública exigente exhaustiva garantista sujeta a normas estrictas de control de calidad y transparencia y en estos momentos como le he dicho

espero si no se interponen recursos que podamos resolver este contrato definitivamente con estos

en la segunda quincena de abril eskerrik asko eskerrik asko

herri senide honen eguneroko errealitatea bai eta haren errealitate instituzionala ere en estos cuarenta y dos años el pueblo

cada saharaui deberá sentirse orgulloso del funcionamiento de sus instituciones nacionales

el pueblo saharaui está más que nunca apegado a sus legítimos derechos a la autodeterminación

potencia ocupante responsable de la represión y el expolio de los recursos naturales del sahara

acaba de emitir una sentencia en la que ha reafirmado que marruecos no tiene

por todo ello instamos a naciones unidas a que promueva sin más dilatación la solución justa y definitiva de este conflicto que pase por el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui mediante la celebración de un referéndum libre transparente

reafirmamos que el frente polisario es el único legítimo representante del pueblo saharaui exigimos a marruecos que lleve a cabo la inmediata liberación

y cese las violaciones de los derechos humanos en sus prisiones y en los territorios ocupados del sáhara occidental eskatzen dugu